baina diru hau herritarrena da porque si no gastáis todo aquello que prometéis a bombo y platillo todas aquellas líneas de ayuda

porque parece que las ayudas que prometéis son de cartón pluma y está claro que cuando se quiere se hace y este gobierno lo sabe no hay más que ver la diferencia

de equipamiento personal en comparación con otras muchas como por ejemplo

las otras las segundas se anunciaron colmaron titulares y no llegaron a gestionarse o a ejecutarse ni en un tercio y de los cincuenta millónes de euros con los que este gobierno completaba los doscientos dieciocho provenientes del estado debéis de ponerlos en marcha el problema no es que no haya solicitantes sino que el decreto del estado no responde a las necesidades de nuestros autónomos de nuestro tejido

que está mal diseñada pero eso no dice que no hay necesidad este gobierno tiene la obligación de responder de acompañar de estar y de ayudar porque persiana que cierra persiana que no abre porque teniendo recursos habiendo necesidades no podemos darnos el lujo de mantener la hucha cerrada herri honek

gracias señora presidenta bueno vamos a hablar de una cuestión que

motivo de debate en pasados plenos

con el grupo proponente para nuestro grupo parlamentario siempre que hemos hablado de esta cuestión hemos tratado de incidir

básica y es que el modo en el que debíamos de salir de la crisis económica producida

que la que se dio tras la crisis financiera de dos mil ocho

desde luego la fórmula de la austeridad no era el mecanismo idóneo a la vista de los sufrimientos

de esas políticas y en ese sentido

sus palabras y su grandilocuencia a la hora en ocasiones

ciertamente retórica en la que ha hablado de presupuestos expansivos incluso

de financiación a pérdida de las empresas cuando realmente las políticas del gobierno vasco a este efecto realmente han sido por lo general más ligadas a deducciones o incluso a avales crediticios más que a líneas de financiación

de coalición en el gobierno de españa hemos tratado de impulsar

que se aplicaran líneas de financiación directa y en este caso

millónes de los que estamos hablando en estos momentos bien es cierto que hemos tenido que hacer un esfuerzo

para que este real decreto fuese modificado no en una ocasión sino en varias tanto para extender

este real decreto como fue el caso por ejemplo de las bodegas de la rioja alavesa como también el reciente o los recientes cambios que se han efectuado

ayer mismo como bien se ha dicho ahora respecto a la flexibilización de las condiciones de acceso

creemos que la política de recuperación económica tiene que pasar por el liderazgo de lo público en este sentido y por no dejar a expensas de la iniciativa privada que fruto del ciclo económico permita volver a los niveles a la pandemia creemos que en este sentido lo público y la administración

tiene que ser una impulsora ya sea a través del uso

que la flexibilización a nivel europeo lo permite y así lo hemos defendido tanto en la tramitación

como en otras ocasiones así como con políticas expansivas de inversión pública creemos que hay que recuperar el nivel de inversión pública

de los niveles de dos mil ocho y en este sentido con respecto a los sectores afectados

por la crisis ya sea comercios empresas etcétera lanzar líneas de financiación directas que no sean exclusivamente líneas de aval crediticio que es cierto que también a través del ico a nivel estatal han sido una de las fórmulas más prioritarias de la recuperación económica pero creíamos que paralelamente y ese ha sido uno de los ejercicios

también se aplicaba en líneas de financiación directa y en este sentido

la propuesta transaccional viene básicamente a plantear que una vez modificado el real decreto que consideramos que efectivamente había ciertos elementos que había que modificar para mejorar y para extender su aplicación más allá de la propuesta

en la medida en que hay una corresponsabilidad y una cogestión con las comunidades autónomas para su aplicación es que haya también una campaña intensa por parte del gobierno vasco para

sufrido pérdidas contables derivadas de la crisis pues cómo pueden acceder a estos recursos financieros y cuáles son los condicionantes que aplican en el real decreto para su para en fin poder optar

de financiación y en este sí en caso de que no sean suficientes incluso haya que

figuran en el real decreto que se haga uso de lo que el consejero

ha verbalizado y es que disponemos de fondos propios y que en ese sentido no habría ningún problema en más allá de lo que

doscientos millónes que corresponderían a euskadi pues que más allá de eso se podrían aplicar nuevas líneas de financiación si hiciese falta y nosotros creemos que

hace meses sigue haciendo falta y por tanto de ahí viene el segundo punto

que el gobierno vasco podría plantear pues líneas de financiación propias pues

que se han hecho por parte de miembros del gobierno vasco entendemos que si son cincuenta millónes la cifra de la que hablaban por qué no a día de hoy teniendo en cuenta que están

ponerlas en marcha ya y que sean efectivas es decir que

en su ejecución y en su aplicación

y por nuestra parte creemos que es una transacción que en principio no debiese de generar problemas para su

que se realice una campaña de comunicación para informar

que están dispuestos a hacer que es básicamente aplicar líneas de financiación directa con fondos propios y en este sentido creemos que no debiese de haber problemas para poder acordar no ha sido posible nos parece que es una oportunidad perdida teniendo en cuenta que ha habido precedentes en el pasado que sí que han concitado el acuerdo

en cuestiones de este calado eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

un número razonable e importante de iniciativas para ayudar a los empresarios particularmente a los autónomos en algunos casos incluso se ha llegado

y con los grupos que apoyan al gobierno hemos hecho iniciativas pues empezamos en prácticamente en marzo en junio incluso en noviembre del año pasado o

noviembre del año pasado también ya presentamos una de las primeras iniciativas y

número de iniciativas relativas al apoyo al empresariado por parte de todos los grupos se ha ido incrementando en los últimos meses pues es que parece que lo que preocupa es

el anuncio por parte del gobierno que fuere en este caso y después de la foto después de la prensa

se han hecho grandísimos anuncios de movilización de grandes cantidades de dinero tanto por parte del gobierno central que ya en febrero de este año pues anunciaba once mil millónes para ayudar a pymes y autónomos

luego el propio gobierno vasco iba a completar una partida específica asignada

de euskadi de poco más de doscientos millónes de euros con una partida adicional de otros cincuenta millónes de euros etcétera

es que las ayudas directas han encallado y lo cierto es que no han cumplido en absoluto su finalidad

apenas un veintitrés por ciento a la fecha del cierre de la primera convocatoria y

existen unos fondos a disposición y luego el problema es la capacidad de ejecución pues yo creo que hay que hacer autocrítica y es sano hacerla

para ello nos van a tener aquí a nosotros es sano yo creo hacer autocrítica y replantear la situación modificar las órdenes y modificar las condiciones el gobierno vasco en este sentido pues ya contrató una serie de interinos para la gestión de este tipo de ayudas aparte

nosotros apoyamos es bueno incluso se añaden actividades económicas adicionales para poder ser para poder disfrutar de ese tipo de ayudas pero cuál ha sido uno de los problemas fundamentales

efectivamente aquí y tengo gran interés por escuchar a los grupos del gobierno uno de los problemas era la redacción o las condiciones que ya imponía el decreto ley por una parte que dejaba fuera a bastantes empresas por la manera que tenía

nosotros esto ya lo comentamos en algún caso es que el decreto creemos que estaba mal diseñado solamente se podía recibir la ayuda

también había problemas para personas que tuvieran deudas con la administración aunque estuvieran ya reconocidas y hubiera un plan de pagos esto suele ser un problema habitual en las ayudas

quien es elegible para solicitar una subvención lógicamente el principal problema que tiene es el de solvencia

que revisaran esta cuestión nosotros hemos hecho un sin número de propuestas relacionadas con los impuestos con la forma de percepción hemos puesto comparaciones que las podemos repetir hasta la saciedad

ya saben que por cada cien euros que

un autónomo las ayudas han sido de veinte euros en el caso de alemania

es decir lo hemos visto con la hostelería nosotros aquí también a los que se les ha dificultado en un contexto complicado no quiero recuperar ese tema pero sí que es cierto

en este caso al empresariado y yo creo que es bueno reconocerlo y sobre todo intentar aprender

una nota de irekia del portal de transparencia que tenían planificado que podría

empresarios los últimos datos es que apenas cuatro mil o cinco mil han podido ser beneficiados con este tipo de ayudas

en fin yo en todo esto sí que creo que como suelo decirle

varios son los argumentos en este caso para

se hizo sin hablar con los colectivos afectados está

costumbre que tiene el gobierno central de aprobar las cuestiones por decreto ley y luego tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia

la única manera de tramitar esa ley es habiéndola aprobado previamente el decreto ley es verdad que nosotros oímos siempre en prensa y tal pues que se va a llegar a negociaciones etcétera pero luego nunca se llevan a cabo esas negociaciones o por lo menos o mejor dicho esas negociaciones no cristalizan porque como saben ustedes señorías la tramitación de un proyecto de ley aunque vaya por el procedimiento urgencia tarda mucho tiempo con lo cual al final estamos

dando un poco bandazos es un problema que el gobierno de españa

es una pena que el gobierno en este caso no escuche el problema es que el partido también del gobierno fundamental o los dos partidos en este caso el pnv también

consejerías también replican el comportamiento del partido socialista en madrid aunque es curioso porque le critican allí por autoritario pero luego aquí emulan el mismo procedimiento es decir

coger o captar la atención mediática pero luego llega el día después de los

lo que demuestra que las ayudas no son lo que el sector esperaba

sin en una planificación inicial si te equivocas tanto en una planificación inicial del número de pero

del número de posibles beneficiarios hombre yo creo que hay que repensar el tipo de ayudas que se están dando yo creo que la falta de previsión ha sido muy grande por parte de ambos gobiernos tanto el central

faltó necesidad no en absoluto el problema es que muchos autónomos se quedaron fuera por no cumplir ciertos requisitos

usar al menos esa partida específica que el gobierno vasco ha puesto a disposición de esta situación

pues para un nuevo programa que ayude realmente a los autónomos

es una cosa muy importante que exista una auténtica coordinación con el gobierno de españa en este caso es que

y eso que comparten socios y partidos lo cierto es que les cuesta mucho coordinarse en una cuestión tan importante como esta segundo hemos pedido también en nuestra iniciativa transparencia no obstante se valora también una parte que contenía la enmienda a la totalidad del grupo podemos y nosotros en ese sentido

en la transacción porque aunque vemos que hay algo positivo pero claro al final la propuesta se ha convertido en hacer una campaña de comunicación

poner en marcha nuevas líneas de ayudas está bien nosotros por eso no votaremos en contra nos abstendremos

involucrar a los sectores afectados por lo menos que haya un trámite de audiencia y luego a partir de ahí legislar en consecuencia por eso nosotros nos abstendremos en esta

presidenta lehendakari consejeros consejeras egun on denoi el consejo de ministros aprobó el doce de marzo de este mismo año un real decreto ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial que movilizaba once mil millónes de euros en ayudas directas a las empresas mediante subvenciones

y refuerzo de su capital que fue convalidado en el congreso de los diputados el veinticinco de marzo las ayudas se dirigían a empresas viables en los sectores más afectados por la pandemia con el fin de canalizar los recursos al conjunto de la economía y reducir el riesgo de un sobreendeudamiento que pudiera lastrar la recuperación económica la norma establece diversos instrumentos para que empresas y autónomos

con proveedores costes fijos y otras deudas financieras y no financieras mejorando así sus balances

estas ayudas directas hay que conjugarlas con moratorias para el pago de impuestos y cotizaciones de la seguridad social además de moratorias para la devolución de los créditos públicos créditos hipotecarios y prestamos sin garantía hipotecaria con entidades financieras el pago de alquileres en el caso de autónomos o personas vulnerables y los socialistas vascos queremos poner en valor que la red de seguridad desplegada por el gobierno de españa

equivale al veinte por ciento del producto interior bruto lo que supone una de las respuestas más elevadas de los países de la unión europea a las consecuencias sociales

la línea de ayudas directas a autónomos y empresas de las que hoy estamos hablando

y tiene como objetivo que las comunidades autónomas concedan ayudas

más afectados por la pandemia y cuyos ingresos han caído más de un treinta por ciento con respecto a dos mil diecinueve

y se emplean para el pago de deudas contraídas por las empresas desde marzo de dos mil veinte

suministros salarios arrendamientos o reducción de la deuda financiera a estas ayudas pueden acceder todas las empresas y autónomos del sector de la hostelería y de la restauración

establecidos en el real decreto ley dos barra dos mil veintiuno y otros especialmente afectados por la pandemia como las actividades de la industria manufacturera relacionadas con el comercio y la hostelería

sectores auxiliares al transporte mantenimiento aeronáutico y actividades relacionadas con la cultura y las actividades deportivas cerca de un centenar de actividades

que amplían la cobertura y el montante de las ayudas con recursos propios en cincuenta millónes de euros más que adicionar a los doscientos dieciocho millónes que nos corresponden a euskadi la asignación de esos doscientos dieciocho millónes ha seguido los mismos criterios

impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad autónoma impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil pueden beneficiarse

que hayan tenido una caída de sus ingresos de al menos el treinta por ciento en dos mil veinte respecto al año anterior y las ayudas cubrirán hasta un cuarenta por ciento de la caída adicional de ingresos de las microempresas y autónomos con hasta diez empleados y un veinte por ciento para el resto de empresas con una cantidad fija de tres mil euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y un rango de entre cuatro mil y veinte mil euros para el resto

y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado con un importe de doscientos diecisiete

y la normativa española ni la normativa autonómica han sido normativas estáticas se han ido adaptando a las circunstancias que la aplicación de esas normativas

con la única finalidad de hacerlas eficaces y aprovechar al máximo los recursos económicos y así con la convalidación del real decreto ley cinco se establecen medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del covid hemeretzi y entre los cuatro ejes sobre los que pivota esta normativa que hablábamos de un conjunto de doce mil millónes de euros está esta línea

a autónomos y empresas por medio de la orden trescientos cuarenta y ocho se concretan los criterios para asignación de ayudas directas a autónomos y empresas la convalidación del real decreto ley seis de veinte de abril supone la adopción de medidas complementarias

para el apoyo financiero a beneficiarios de ayudas y prestamos concedidos por el estado y se habilita a las comunidades autónomas de forma que puedan tener un margen de flexibilidad para añadir sectores elegibles que reciban estas ayudas un hecho importante porque euskadi a esos noventa y cinco cnae añadió setenta y ocho

el dos de junio se firma el convenio entre el ministerio de hacienda la agencia estatal de administración tributaria y la comunidad autónoma de euskadi para la aplicación de lo establecido en el artículo cuatro punto cuatro de ese real decreto ley

y el gobierno vasco publica el decreto ciento cincuenta y cinco por el que se aprueban las medidas extraordinarias en relación con la gestión la tramitación y el control económico de las ayudas directas a autónomos y empresas disponiéndose también en la orden de veintinueve de junio la aprobación de las bases para conceder

directas por tanto el gobierno también el gobierno vasco

está añadiendo actividades económicas adaptándolas a las necesidades de euskadi todas las normativas la española y la autonómica

en las necesidades y para conseguir una mayor eficacia y eficiencia de las ayudas que se estaban planteando para llegar al máximo de sectores económicos afectados

enmienda transada entre los nacionalistas vascos socialistas vascos y euskal herria bildu el veintisiete

de las subvenciones establecidas para apoyar a los sectores afectados por la covid diecinueve los socialistas vascos la consideramos cumplida cumplida en todos sus términos en todos en los cinco puntos el gobierno ha recibido efectivamente

a estas ayudas eliminados los desistimientos y las duplicaciones se han producido setecientos seis denegaciones y han resultado válidas cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco las ayudas concedidas han sido mil ochocientos veintisiete y se

de algunas otras y con el último decreto

real decreto ley número diecisiete y con las órdenes correspondientes por parte del gobierno vasco que hoy se publicaban efectivamente el contenido el objeto

va a hacer que se amplíen esas solicitudes y hoy como decía la iniciativa de euskal herria bildu también está superada la original excepto en un punto ustedes pretendían y pretenden en la enmienda que han transado con elkarrekin podemos izquierda unida

que los cincuenta millónes que estaban incluidos en esas ayudas europeas sean realmente se excluyan de ahí y se dirijan a lo que nosotros

y usted lo sabe tan bien como yo no son las reglas del juego porque esos dineros

no vienen del cielo esos dineros vienen de europa y por tanto hay que ajustarse al marco normativo europeo esto no puede ser un saco de la bolsa los cincuenta millónes y lo pongo en lo que yo considero que es más urgente o prioritario

y usted lo sabe por eso no funciona que los plazos puedan ser los que nosotros queramos los plazos tienen que ser a treinta y uno de diciembre se da cuenta de cuáles son los resultados eso es y ese es el problema de intentar sacar ahora unas ayudas de la manga como el conejo de la chistera me saco los cincuenta millónes

y aquí lo autonómico hacemos lo que queramos ustedes son bien conscientes y son el ejemplo palpable de que cada vez que se han traído aquí las ayudas

con el autogobierno en marcha con todas sus instrumentos y herramientas al servicio de la ciudadanía ustedes se han opuesto siempre a todas las ayudas en materia sanitaria en materia económica en materia de empleo en cualquier asunto que viniese como consecuencia de la covid diecinueve ustedes

en contra de esas ayudas esa es su imagen de lo que es el autogobierno ustedes van en contra del autogobierno de euskadi aquí no vale poner y equiparar ahora

contra qué bien podríamos hacerlo los vascos no es verdad no es verdad ustedes se han opuesto

porque todo es insuficiente porque el gobierno vasco no ha trabajado pronto y bien y ustedes siempre se han considerado la alternativa planteando planes que son humo y que no es ninguna alternativa realista a las necesidades de quienes han sufrido las consecuencias de la covid diecinueve en los sectores económicos
más afectados por la pandemia gracias eskerrik asko corcuera andrea

decididas por el gobierno central refrendadas por el congreso de los diputados del real decreto cinco barra dos mil veintiuno pensamos y así lo dijimos que podían no ser eficientes que podían no ser eficaces dado que entendíamos que podían constreñir en exceso la tipología de posibles beneficiarios de las ayudas y que podían no tener en cuenta la realidad del tejido económico de nuestra comunidad autónoma

el resultado del programa de ayudas por lo menos hasta ahora no está siendo el deseable es cierto que será un número de solicitudes inferior a lo esperado y por lo tanto un nivel de ejecución lógicamente

y por eso se han estudiado y se han ido dando cambios desde el gobierno central

al ordenamiento legal de esta comunidad se ha dicho ya hoy mismo se abre un nuevo plazo tras la última

el plazo de solicitudes para aumentar el periodo de deuda computable así como las pérdidas contables estimamos que este

dichas solicitudes y evidentemente como consecuencia de ello las cuantías concedidas

pues en estos momentos yo personalmente lo desconozco y por prudencia

de esas ayudas que va a estar directamente relacionado con el número de solicitudes que se presenten deseamos que sea

porque eso querrá decir que más fondos han llegado a nuestro tejido económico

ampliar el número de empresas y personas autónomas beneficiarias pero la realidad es que se ha aprobado lo que se ha aprobado

el departamento de economía y hacienda que le recuerdo es gestor no diseñador

y hemos alcanzado un acuerdo fundamentalmente por la petición que se hace

de crear una nueva línea con recursos de ayudas con recursos propios del gobierno vasco que venga a atender las necesidades de aquellos sectores que no han podido beneficiarse de las ayudas contenidas

modificaciones que se han ido produciendo por cierto hace unos días esta cuestión se ha vuelto a debatir en el congreso de los diputados y que yo sepa

ciertamente el mecanismo legislativo el vehículo elegido por el ejecutivo central para modificar el real decreto cinco barra dos mil veintiuno

una disposición adicional en el real decreto ley que nada tenía que ver con lo que debatimos hoy

cuando se debatió en el congreso el primer real decreto ley sobre el que estamos hablando

ez zuen parte hartu es más alguno de sus diputados votó a favor no sé si por error o para ser el ciento setenta y siete que hacía falta

gure artean en nuestra opinión no vemos factible articular

y tampoco vemos adecuado dotarlo con unos fondos que en todo caso están pensados para apoyar otra convocatoria que a día de hoy sigue abierta alguien podría decir

cambien las condiciones por ejemplo ampliar la convocatoria más allá del treinta y uno de diciembre pero lo que ocurre es que

el día treinta y uno de diciembre está establecido por el marco temporal comunitario y el marco temporal estatal como la fecha tope para ayudas de este tipo un marco temporal especial para ayudas de estado en este caso destinadas a respaldar la economía en el contexto del covid

si este marco temporal no varía y a día de hoy parece que no va a variar las reglas para el diseño de ayudas de subvenciones

pierden el paraguas legal bajo el que han podido ser concedidas y volvemos a la situación anterior a la pandemia vuelven a operar las normativas anteriores en materia de ayudas de estado

del tratado de la unión que es la que ha posibilitado que se tomen este tipo de decisiones y que se diseñen este tipo de programas de ayudas

dentro de contando con el día de hoy cuarenta y nueve días hábiles

si no se adopta otra decisión por parte de la comisión se vuelve a la normalidad también en este aspecto y a partir de esa fecha si no se prorroga ese paraguas es muy probable que todos y todas

tengamos que resetearnos porque la actual política de ayudas que hasta ahora ha sido positiva e imprescindible para los sectores de nuestra economía más afectados por los efectos de la covid diecinueve

fórmulas otras fórmulas y líneas diferentes hasta las ahora empleadas volvemos a tener que comunicar

al marco jurídico anterior a la pandemia insisto si no se cambia ese marco temporal

si hay cambios en el marco temporal decidido por la comunidad por la comisión y si hay cambios en el marco temporal estatal pues podríamos estar hablando de otras cuestiones

gracias señora presidenta buenos días señorías buenos días lehendakari consejeros

del impacto del estado de las autonomías en la gestión de la crisis tanto sanitaria como aquellas que son sus derivados es evidentemente una fotografía nítida de lo que realmente ha sido la cogobernanza es decir descoordinación confusión

también ha sido crisis y pobreza no es de recibo que hoy estemos valorando el mayor o menor éxito de una orden de ayudas a empresas y autónomos afectados por la pandemia fechada además el pasado mes de junio y adecuada un mes después por no ser competencia de este gobierno

el mayor o menor éxito de estas iniciativas o iniciativas de este tipo ya no dependen tanto del contenido de la propia orden o decreto como de la estructura administrativa de este país de un reparto competencial y comprensible que entorpece la consecución de los objetivos que se dicen perseguir

la que mejor suena evidentemente es la del partido popular sabemos que está condenada a no salir airosa pero es la más coherente de cuantas se presentan aunque como ya he comentado este tema debería de sonrojar a los gestores de la crisis ya sea tanto en el gobierno de españa como en el gobierno vasco y deberían avergonzarse por estar hablando un veinte de octubre de empresarios y autónomos a los que las ayudas no llegan tan solo han llegado a cuatro mil personas es muy curioso

por estar considerando en este momento incrementar partidas destinadas a personas y trabajadores que en muchos casos ya no tienen negocio ni puesto de trabajo que salvar qué vamos a hacer ahora con ellos en resumen el actual reparto competencial ha sido más un freno que una garantía de buena gestión y hoy estamos ante una prueba más tenemos otras como el baile de medidas restrictivas o los diferentes planes de vacunación

por la diversidad de necesidades por no saber a qué órgano acudir cuál era el competente por obligar a empresarios y autónomos a hacer doctorados nada menos para saber

me tengo que dirigir eso es algo fácil de modificar y yo creo que si hay interés por parte de la administración en modificar y exponer mucho más sencillo este trámite es algo viable

de cuántos empresarios autónomos y trabajadores están en situación de necesidad del volumen de ayudas necesarios para ofrecerles un presente y un futuro

el imprescindible para cubrir necesidades reales y no solamente previsiones como se está haciendo en todas las intervenciones hasta ahora muchas gracias

a sabiendas de que no podemos modificar no tenemos tiempo suficiente como para modificar

de diciembre perdón agosto ya se nos pasó a sabiendas de que no había tiempo para cambiar lo que proponíamos es

fondos propios se plantee eso y el año pasado a doce trece de noviembre

una convocatoria y a treinta de diciembre otra turístico si se quiere se puede y por otra parte escucho que la unión europea pretende

pero hay unas necesidades estructurales y cuando nosotros hemos propuesto

el punto de cambio planteamos que los sectores económicos que más desfavorecidos

han salido tenemos necesitamos modernizar el sector del comercio y hay ciertas ayudas que tienen

y tienen cabida en el ordenamiento jurídico y en las necesidades que hay

fomentar la regeneración urbana por ejemplo el programa hirigune que iba fomentado

era un programa muy interesante y lo que proponemos nosotros es que

que es que después de la pandemia hay sectores que anteriormente ya lo estaban pasando mal y que han salido peor y que teniendo recursos económicos como los que tiene el gobierno vasco y planteábamos porque

adherir a los doscientos dieciocho los cincuenta que se pongan en manos para el fomento de aquellos sectores económicos que han salido más

egunkarietan ere jaso zen el gobierno vasco propone el gasto más alto de su historia para combatir la pandemia

eskerrik asko señora presidenta a mí me parece que denostar

se hace por parte de ciertos grupos incluso con el que hemos transaccionado la movilización de recursos públicos que ha hecho

pandemia es del todo en fin aventurado teniendo presente además y se ha dicho que la mayor parte de las medidas que se han puesto en marcha para paliar

parlamentarios aquí sostenidos en lo que respecta a los grupos que están en el congreso

costó y digo a nuestro grupo le costó muchísimo sacar adelante en el seno del propio gobierno de coalición porque había

declaraciones públicas por parte de miembros del gobierno de coalición en relación con lo poco eficaz que era la aplicación de líneas directas no de los condicionantes del propio real decreto sino la articulación y la puesta en marcha de políticas de apoyo directo a los afectados por la crisis denostar

muy aventurado en cualquier caso sí que es cierto y además públicamente lo hemos hecho o lo hemos dicho que el real decreto era necesario adaptarlo y así ha sido

si desde el primer momento hubiese dispuesto de la flexibilidad de las condiciones que finalmente han tenido que aplicarse en el real decreto probablemente estaríamos hablando de otra cosa en cuanto al número de perceptores

de la línea de financiación que en principio estaba prevista aplicar o materializar porque de hecho nuestro grupo en un momento inicial planteaba

a nivel del estado que fruto de las propias negociaciones en el marco del gobierno de coalición tuvimos que rebajar

creemos que el diseño del real decreto es verdad que hubiese podido ser

bastante mejorable y que si hubiese sido así pues como bien decía el número de perceptores hubiese sido otro no nos arrugamos a la hora de reconocer en este sentido

de desarrollo del real decreto creemos que si hubiesemos dispuesto desde luego de la mayoría en el gobierno de españa probablemente y también

distinta en cualquier caso creemos que por parte del gobierno vasco haber movilizado mayores recursos y también la aplicación de líneas directas de ayuda y no solo haberse quedado en declaraciones respecto a la optimización de los recursos venidos por parte del real decreto sino que el gobierno vasco también en este sentido debiese de haber sido protagonista y haber además de incentivos y deducciones y créditos de aval haber planteado también líneas de financiación directas que hubiesen dispuesto

óptimamente a los que las necesitaban es una pena en cualquier caso que no hayamos conseguido una transaccional teniendo en cuenta que desde luego

imposibilidad por plazos de la modificación del real decreto y retirado ese punto

nos hemos limitado a una campaña como decía de movilización o de pedagogía del real decreto entre los perceptores susceptibles perceptores y en su caso de la posibilidad de movilizar

para generar nuevas líneas de apoyo a los necesitados en este sentido

es claro que los grupos de esta cámara que tienen también representación en otras instancias pues pueden estar como no puede ser de otra manera de acuerdo con que es necesario dotar de ayudas al empresariado

lo que no podemos estar o quizá podemos tener posturas algo más distantes esa es la forma de hacerlo pero yo creo que

muchos sentidos por supuesto pero sobre todo el punto de vista digo de gestión de una serie de ayudas yo creo que aquí lo que deberíamos sacar es una lección

nosotros siempre hemos sido partidarios desde nuestra posición lógicamente como grupo de la oposición

que sean positivos para el empresariado para las pymes que es el músculo económico es el que realmente crea riqueza en esta tierra nosotros llegamos

que toda la oposición no es constructiva nosotros el veintisiete de noviembre

que sustentan al gobierno precisamente sobre esta cuestión

a pymes profesionales autónomos que establezcan nuevas condiciones de acceso a prestamos entre otros extremos que el periodo de cadencia de los mismos pase de uno a dos años que el plazo para su reintegro de cinco a ocho años que se cree una línea específica de apoyo a sectores más afectados etcétera etcétera

yo creo que esto es una cuestión en la que hay bastante prisa porque cada día que pasa

en españa y en euskadi lo cierto es que difiere mucho

mientras que desde marzo de dos mil veinte a nivel nacional

autónomos más euskadi tiene casi setecientos autónomos menos es que la crisis de los autónomos

ha sido el remate para muchas de ellas y les ha afectado muchísimo pero es que ya

los últimos periodos no se crean desde el año dos mil dieciocho no hay un saldo positivo de creación de o de autónomos nuevos en euskadi y en el dos mil dieciocho

quiero decir con esto que los autónomos son siempre los grandes olvidados y eso que son el músculo financiero

yo creo que esta oportunidad que se nos ha planteado ya que había algún acuerdo en este caso incluso negociación de posibles fondos europeos para ayudar al empresariado les estamos haciendo no un flaco favor sino que les estamos realmente fallando antes el señor atutxa ha dado algunos datos él ha dicho que hombre que las ayudas

que casi les ha puesto fecha de defunción hombre es verdad que hay un marco presupuestario efectivamente

mejor puede parecer poco pues a una gran empresa pero evidentemente para un empresario esa cantidad

si realmente se cree en la actividad económica libre si realmente se cree

lo que hay que hacer es ayudarles de qué manera pues mire primero estableciendo un marco jurídico que sea claro porque lo que está realmente claro lo que es absolutamente transparente es que esta serie de legislaciones cruzadas en las que no queda claro uno establece un marco el otro lo amplía el otro lo reduce en fin yo creo que hay que tener un marco claro claridad luego hay que combinar ayudas directas con incentivos les doy algunas ideas

preparando ahora mismo en la consejería correspondiente pues que se eliminen los criterios de la clasificación actividades no es que el estado puso poquitas el gobierno vasco ha ampliado ha sido generoso bueno pues pónganlas todas

claridad y sobre todo luego claridad también claridad administrativa también que haya claridad administrativa en esta cuestión que yo creo que es

una política de incentivos que combine también incentivos fiscales ayudas directas lógicamente con fecha de caducidad que combine incentivos fiscales y que tenga una política también de transparencia y sobre todo de facilidad de verdadera ventanilla única ayudaría mucho a los empresarios mucho más que este tipo de ayudas y que muchos prestamos que al final dan casi más trabajo

gracias presidenta mire señor iriarte se ha pasado usted cinco minutos los primeros cinco minutos de su intervención

esta pandemia hablaba usted de que

debían de ser absolutamente desconocidos por el gobierno vasco y por el gobierno de españa vamos a ver por poner un poco las cosas en orden y situarlas tanto el gobierno de españa como el gobierno vasco cuando trabajan para ayudar a sectores determinados en este caso para los sectores más afectados por la pandemia lo hacen de forma ordenada y prudente aquí no sale una ayuda por cuestión de ocurrencia las cosas se estudian y luego se analizan y se ve si hay presupuesto y si no hay presupuesto en el caso de la pandemia como así ha sido el caso del presupuesto para dos mil veintiuno que recuerdo

con su apoyo y recuerdo que tampoco contó con el apoyo del partido popular así que cuando hablamos de dineros situemos también las cosas en su justo orden

cómo que no se ha respondido de la forma debida responder es querer que todo vale nos sacamos el dinero ya veremos de dónde y prometer lo que no es posible cumplir eso es lo que usted nos está diciendo porque bildu se ha planteado

humo se ha venido aquí con el farol y con la pancarta de la alternativa y desde el minuto uno de esta pandemia cuando este parlamento estaba disuelto cuando funcionaba la diputación permanente y hasta la creación del nuevo gobierno

ustedes solamente han planteado humo no son verdad la alternativa utilizan a los sectores y a los colectivos de manera demagógica y populista

de cómo viven como si nosotros los demás estuviesemos fuera de una realidad

eso ha sido con comercio con turismo con hostelería cuando se ha planteado en este parlamento ayudas directas

de comercio turismo y consumo ustedes no apoyaban no la han apoyado nunca nunca desde que estamos

legislatura y decía los retos no se afrontan en solitario oiga no pero hay que ponerse a disposición pero a una disposición real aquí no vale con tender la mano y cuando te lo van a coger la retiro eso no vale señor iriarte y a eso ha estado usted jugando y a eso ha estado usted y su grupo

medallas que no les correspondían porque no se puede generar vagas expectativas ante colectivos que lo están pasando mal y ustedes sí lo han hecho ustedes sí lo han hecho en todos los niveles institucionales

de servicios planteada desde los ayuntamientos desde las diputaciones

ustedes no siempre el más a más todo es insuficiente nada vale pero luego a la hora de la verdad de contar con el apoyo presupuestario ustedes se lavan las manos y huyen y huyen ese es su problema

o no votaron en contra del presupuesto o no planteaban ustedes ayuda para la hostelería que incluso ni cubría sus necesidades

porque están las actas en la comisión es verdad decía

de elkarrekin podemos izquierda unida que está muy bien esto de ponerse de perfil cuando uno está de socio de gobierno y mire usted su grupo convalidó el real decreto cinco barra dos mil veintiuno de doce de marzo lo convalidó y el señor echenique no dijo nada en contra señor soto nada

nada así que no vengamos aquí con historias raras es verdad

supone que a veces hay que pasar de la denuncia a gobernar a gestionar

pero no vale ponerse de perfil en algunas cosas como en esta historia del real decreto

de dos y si se convalida se convalida por la voluntad de varios más en el congreso de varios grupos políticos parlamentarios más y eso es lo que ha ocurrido

y que aquí unos vamos de listos y una vez visto todos listos

eso no cuela el café para todos no vale cuando las circunstancias son diferentes cuando los sectores son muy distintos eso no vale así que no juguemos

decir que el gobierno de españa ha puesto una red de seguridad que equivale al veinte por ciento del producto interior bruto para evitar un daño estructural permanente no es mentir y decir que las ayudas españa suponen

por encima de francia por encima de italia no es mentir eso está ahí así que

el tono que utilizan para decir ciertas cosas y poner a otros en la cuneta este gobierno

garantizar la salud garantizar la salud de la ciudadanía vasca recuperar la actividad económica y el empleo y sin dejar a nadie atrás en ese empeño estamos los socialistas vascos apoyando a este gobierno desde el minuto uno

que si se quiere se puede y es una frase que en algunos casos puede tener su valor y en otros no yo quiero correr cien metros en menos de diez segundos usted cree que puedo yo creo que no me miro al espejo y yo creo que no

y luego otra cosa es que las diga quien no tiene que gestionar quien no tiene que planificar quien no tiene ningún problema con cumplir toda la legislación en vigor etcétera y trasladar el problema

no siempre ha puesto ejemplos de ayudas que se han adoptado bajo el paraguas europeo y bajo el marco temporal estatal que en esos momentos

a fecha de hoy están en vigor pero a partir del treinta y uno de diciembre

no sé si me ha entendido bien ha dicho que poco menos que ha afirmado que

sé hasta cuándo está en vigor el paraguas actual no sé lo que va a pasar

no me llama no me escribe para preguntarme estas cosas a este humilde parlamentario no no sé si a otras personas sí de esta cámara pero a mí no hasta ahora por lo menos igual la cosa cambia a partir de el paraguas se cierra a partir del día treinta y uno

y luego volvemos a los mecanismos anteriores y los mecanismos anteriores todos y todas los conocemos no eran automáticos requerían de un estudio en bruselas

te podían decir que no ese es el mecanismo anterior

del dos mil veintidós si no hay cambios en ese nivel señor soto me ha parecido entenderle que igual seguramente

poco menos que afirmar que aquí no ha habido ayudas directas que no las ha habido eso a mí me asusta y me preocupa porque señor soto dónde ha estado usted metido estos últimos dieciocho meses

si me pongo a repasarles todo el listado

no voy a llegar al quinto programa y la señora presidenta me va a retirar

me preocupa porque yo le he visto físicamente en esta cámara pero no sé dónde ha estado metido no lo sé jaurlaritzak betetzen ari da

señora presidenta señor lehendakari señores consejeros y consejeras

de una cuestión que creemos que es muy relevante y fundamental

hace un par de semanas conocíamos los pandora papers pero

la serie de filtraciones que se han dado ligadas a escándalos que nos muestran las cloacas fiscales globales

de operar y en definitiva este último capítulo prueba que los ricos los acaudalados

no pagan impuestos evasión fiscal elusión fiscal erosión de la base imponible y traslado de beneficios o deducciones

varias caras del mismo fenómeno los ricos y

no pagan impuestos no pagan impuestos y lo consiguen por distintas vías y también hay que decirlo por una arquitectura

arquitectura internacional que tiene también su cierto reflejo en euskadi citando el plan de lucha contra el fraude fiscal el fraude delictivo antisocial e insolidario que ocasiona un reparto inicuo de la carga fiscal entre las personas que cumplen y las que no cumplen la normativa tributaria evidentemente algunos de estos elementos tienen como han demostrado

y por tanto las soluciones deben buscarse y abordarse también a escala

y de hecho en el ámbito internacional se están haciendo en los últimos años más que nunca estrategias conjuntas contra el fraude a una escala mayor como por cierto también recoge

el fraude en sus primeras páginas sin embargo hay mucho que se puede y se debe hacer aquí también en euskadi para paliar

el fraude fiscal en cualquiera de sus muchas manifestaciones un problema que creemos que es crónico o mejor dicho cronificado

de atajarla lamentablemente en este ámbito también los datos que tenemos son escasos y en ocasiones también a nuestro entender fiabilidad cuando no directamente desfasados pero los que tenemos hablan por sí solos voy a referirme a dos informes que además se trasladaron en esta cámara en comparecencia un informe de serna zubiri y vallejo y el más reciente

que decía así que la economía sumergida en euskadi representa

lo que representaría un veinte por ciento de la economía total y cuánto desde entonces se ha complejizado la ingeniería fiscal

para desplazar las bases imponibles a países con menores tasas impositivas cuántos vascos y vascas están en los llamados

cito literalmente el primero de estos estudios

inmediata lo más razonable es aceptar que el fraude se puede reducir a la mitad y este informe es de hace diez años y que este objetivo se puede alcanzar no de forma instantánea

del fraude los órganos con los que contamos y esto era esto se decía así también en el informe están infrafinanciados y en muchas ocasiones

y coordinados con otros organismos y esta ya es una apreciación propia del grupo parlamentario en general el respaldo político con el que cuentan es escaso desde elkarrekin podemos ezker anitza presentamos esta iniciativa que

tiene como principal objetivo demostrar que las instituciones vascas deben tener un firme compromiso de acabar con esta lacra y que cuenta y deben contar

de forma decidida la transaccional a la que hemos llegado con eh bildu tiene como objeto

para lo verdaderamente importante creemos que tiene que haber técnicos y técnicas que puedan centrarse en investigación de los fraudes más sofisticados

policiales y judiciales que sea de forma sistemática planificada y cuantificable con planes anuales estudios de impacto indicadores que den cuenta año a año de que este tipo de delitos se van reduciendo y que los agujeros de las haciendas forales también se van reduciendo y todo esto bajo la mirada atenta el paraguas y la iniciativa del gobierno vasco

a los agentes con los que cuenta la sociedad vasca agentes sociales políticos y económicos que con una interlocución

e impulsar sobremanera la lucha contra el fraude fiscal la falta de transparencia la sensación de aislamiento no permite combatir colectivamente

de interlocución las haciendas los ámbitos de coordinación y la comisión tienen que ser capaces de asumir compromisos reales y duraderos con estos agentes compromisos deberes

porque el bienestar de las personas y el desarrollo social futuro van a depender en gran medida de que nos dotemos de un sistema fiscal justo equilibrado y redistributivo

proponemos en la iniciativa entre otras cosas aumentar

y también de inspecciones aumentar las partidas económicas en función del aumento de recursos

mejores bases de datos extra fiscales crear una policía tributaria que trabaje coordinada con el resto de instituciones investigar las rentas no salariales más altas y priorizar los delitos más graves creando como decía

que ya por desgracia se están utilizando por ejemplo contra el fraude teórico fraude

que junto con las administraciones vele por el cumplimiento de las medidas adoptadas y de los compromisos adquiridos por estas luchar contra la elusión fiscal

para pagar menos impuestos por todo ello creemos que es fundamental que los grupos de esta cámara apoyen esta iniciativa si no complementa al menos algunos de los puntos en los que podríamos estar todos de acuerdo

una de las citas que figuraban en uno de los informes que he mencionado antes decía

fiscal deslegitima al estado para exigir el pago de impuestos si el estado no hace todo lo posible para que todos paguen cuál es su legitimidad moral para exigir el pago a quienes están más controlados

no se les puede exigir legítimamente que paguen es hora de atajar este problema y que los que más tienen empiecen a pagar lo que les corresponde

con la enmienda presentada por el partido popular ciudadanos por nuestra parte nos abstendremos

se recoge una serie de los puntos que figuran planteamientos que son perfectamente asumibles

que no consideramos o que no compartimos con eh bildu agradecerle la voluntad de acuerdo y lo fácil en este sentido que ha sido

en este caso imposible transaccionar pero estamos dispuestos a trabajar en este sentido en la medida de lo posible en futuras iniciativas y creemos además

combatir el fraude fiscal aunque luego en lo que respecta a las políticas materiales y concretas seguramente

ha traído a consideración de esta cámara una iniciativa relativa a la lucha contra el fraude fiscal es una iniciativa

casi un añito hace ya que se trajo que se registró

algunos de los puntos votaremos también a favor de algunos de los puntos que son los puntos originales que incluía

la de elkarrekin podemos pero yo creo que sí merece la pena hacer unas reflexiones sobre lo que implica el fraude y la situación en la que nos encontramos entiendo que el gobierno si no ha presentado enmienda

tienes dos opciones votar a favor de la nuestra que yo creo que es bastante razonable o podría también

de casi todas pero bueno a ver si le consigo persuadir en este pequeño intercambio de pareceres lo que dice el señor soto o como ha comenzado el señor soto el fraude fiscal es

por parte de los agentes privados personas empresas etcétera

el señor soto suelta estas frases que entiendo que pretenden ser titulares de que los ricos y las grandes empresas no pagan impuestos hombre

los ricos pagan un marginal relativamente alto es decir una proporción superior

y las subvenciones y las empresas también a pesar de que oiga pues es verdad que hay empresas que a través de estructuras de ingeniería fiscal pues tienen un tipo efectivo relativamente bajo pero vamos

incluso ese informe establece que la gran mayoría de las empresas tienen un tipo efectivo en torno al diecisiete por ciento y las pymes superior cosa que sí que habría que corregir en torno al veinte por ciento cuando el impuesto de sociedades está en el veinticinco como usted sabe o el treinta el tema de fondo es que en el fondo sí que hay una sí que hay una

unos ciertos incentivos lógicamente por parte de las grandes empresas que tienen la capacidad de montar estas estructuras y las pequeñas evidentemente pues no está a su alcance lo mismo sucede con los que usted llama los ricos las personas que tienen

hasta qué punto el establecer unos tipos marginales que pueden rozar ya prácticamente el cincuenta por ciento lo cual algún tribunal por ahí ha dicho que eso rozaría la expropiación pues es algo conveniente es decir hasta qué punto siempre estrujar a las rentas más altas pues puede acabar haciendo o

todo el sistema y provocando lo contrario de lo que se buscaba que es lo de siempre que al final son las clases medias las que soportan la mayoría de la carga fiscal que eso es lo que acaba sucediendo cada vez que

algunas de su grupo tendentes a subir los impuestos a los ricos porque todo el mundo sabe que los ricos son los malos y por tanto esos son los culpables

hombre yo creo que volviendo un poco más a lo que es la propuesta que se ha establecido lógicamente el fraude fiscal hay que hay que atajarlo lo que pasa es que frente a esto también surgen las opciones cuáles son las mejores opciones cuáles son las mejores políticas públicas para atajar el fraude fiscal pues mire en primer lugar

vivir en una isla es decir estas cuestiones y sobre todo si estamos hablando utilizando los argumentos del proponente

empresas estamos hablando de personas con alta capacidad económica que tienen la posibilidad precisamente

estructuras internacionales que les permitan pagar muy pocos impuestos

europeo pues tiene que haber unos acuerdos internacionales

pero también eso tiene que ser puesto en relación con qué ofrecen también estos países una

yo creo que en materia de seguridad jurídica el gobierno español tiene mucho margen de mejora muchísimo margen de mejora ya no voy a hablar de los temas de las renovables etcétera pero

que dicen muchos inversores internacionales que les preocupa de españa precisamente es esa falta de seguridad jurídica que se plantea aquí te puede cambiar perfectamente no solo el tema impositivo

la propia las propias características o el marco jurídico de tu empresa de un día para otro por eso yo creo que es

una estructura con una garantía de una seguridad jurídica sobre todo para los inversores luego hay que predicar también con el ejemplo las administraciones tienen que establecer unos sistemas de recaudación que sean lógicamente efectivos y eficientes y luego tienen que establecer unas políticas de subvenciones que también sean efectivas y eficientes y luego hay que pedir cuentas a todo el mundo que incumple

al que no es rico pero que ha recibido una subvención o al que se hace pasar por otra persona para cobrar una ayuda etcétera etcétera todo eso hay que hacerlo todo eso hay que hacerlo es decir al final y aquí me recuerda un poco la historia que sucedió a finales del siglo diecinueve en suecia en suecia cuentan los libros de historia económica

ya saben ustedes que en muchos países del norte de europa cualquier ciudadano puede consultar la declaración de hacienda del vecino y el vecino sabe que tu le has consultado la declaración de hacienda

de un día para otro a uno de estos niveles pero sí creo que la transparencia

la transparencia evidentemente es importante yo por eso en la iniciativa que me parecía de interés

el órgano de coordinación tributaria es verdad que ya en alguno pues sí que ha utilizado por ejemplo las bases

me quedaría implementar una serie de criterios adicionales sobre las

en materia de fiscalidad y algún tema antifraude pero bueno ha empezado a hacerlo y el órgano de coordinación tributaria creo que es un órgano que sería de gran interés para que desarrollara o para que coordinara también

al resto de organismos con competencias fiscales que en el caso de euskadi como todos saben señorías es bastante complejo pues una serie de propuestas todo ello

entre estos distintos órganos pero la conclusión fundamental de este debate yo creo que es evidentemente no creo que ningún grupo

del fraude fiscal ya venga de empresas ya venga de personas particulares

lo que creo que discreparemos lógicamente son en las medidas pero es que en esas medidas yo creo que todas las administraciones tienen que actuar de manera muy coordinada y con esto voy terminando en primer lugar desde un punto de vista internacional sobre todo el marco ideal es la ocde establecer

el número de estados para ir reduciendo el número de estados que anualmente suelen ser incluidos en los que se llaman

en realidad son refugios no paraísos fiscales que habría que hacer eso evidentemente

europa que tiene unos estados que mantienen un alto nivel de gasto público a través de sus servicios públicos y sociales para mantener un nivel de igualdad social relativamente alto en comparación con otros países pero claro luego contribuyentes que podrían serlo y en los que en parte descansa

ese tipo de gasto público pues podría lógicamente buscar otros países que sean más atractivos qué es atractivo de europa pues mire la seguridad jurídica donde nosotros en españa fallamos bastante me remito a una situación muy reciente que ha salido en la prensa sobre un directivo

española dedicada a la energía eléctrica que ha decidido que igual se lleva unas inversiones muy cuantiosas al reino unido

la falta de seguridad jurídica lógicamente luego tiene sus consecuencias y luego finalmente aumentar también la transparencia y sobre todo aumentar los procesos de rendición de cuentas yo creo que eso es fundamental

por establecer un marco común que luego sea implementado de arriba abajo establecer unas condiciones que puedan aparecer inicialmente muy estrictas muy nobles etcétera en un marco reducido como puede ser el caso de euskadi

hacia otros lugares que puedan resultar más atractivos por eso es fundamental aquí

la coordinación entre administraciones muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

somos conscientes como ya se ha mencionado del trabajo que se viene realizando en contra del fraude fiscal y de la importancia que ha tenido por ejemplo en los últimos años

no solo desde diferentes fuerzas políticas por supuesto desde euskal herria bildu sino por los propios

en la lucha contra el fraude fiscal pero ello no es óbice para que creamos que la lucha contra el fraude fiscal en esta lucha debemos de dotarnos de más herramientas

todas las herramientas de más herramientas y de una participación activa de todos los agentes implicados queda camino por hacer y desde euskal herria bildu en varias ocasiones hemos puesto encima de esta mesa pasos a tomar en ese camino y sin duda haciéndolo de aquí en adelante porque creemos firmemente que la lucha contra el fraude fiscal es la lucha a favor de los servicios públicos y el desarrollo de una sociedad avanzada y cohesionada porque el fraude fiscal nos afecta a todos y a todas

es lo que nos falta luego a todas para poder hacer políticas públicas por ejemplo en sanidad en educación en servicios sociales

económico porque debemos dotarnos de todas aquellas herramientas que no solo nos permitan detectar el fraude que ya se ha perpetrado sino que nos permitan prevenirlo que nos permitan incluso evitarlo porque se trata de conocer el máximo posible en relación al fraude porque solo así podremos enfrentarnos a él y tan importante como identificar el fraude fiscal y actuar contra él

y las actividades más proclives a ello las vías y métodos más utilizados en definitiva la ruta del fraude y cómo prevenirlo eso es fundamental en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal eta hori guztian sakontzeko tresnak eta baliabideak jarri behar dira mahai gainean gaurko proposamenean

gracias presidenta han sido muchas las iniciativas y debates

tanto en sesión plenaria como en comisión en relación con la fiscalidad y el fraude fiscal y si algo hemos coincidido todos los grupos en los distintos debates dos

es una de las herramientas más importantes para lograr mayor igualdad solidaridad y justicia social una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa

el mantenimiento de los servicios y de las prestaciones para redistribuir eficazmente la riqueza entre la población y para impulsar el crecimiento y la creación de empleo por tanto importante destacar que siempre hemos coincidido en el fondo de esta cuestión los socialistas vascos hemos estado comprometidos con la lucha contra el fraude fiscal desde el principio fue precisamente en el monográfico de fiscalidad de dos mil trece donde se aprobó por unanimidad la creación de la comisión de lucha contra el fraude fiscal

porque solo es posible dar la batalla a esta lacra del fraude fiscal desde la estrecha colaboración interinstitucional esta comisión como saben

planes anuales conjuntos de lucha contra el fraude y la emisión de informes anuales con los resultados obtenidos hasta la fecha se han aprobado siete planes conjuntos de lucha contra el fraude fiscal y se han presentado los seis informes anuales correspondientes con un reconocimiento implícito de que la lucha contra el fraude fiscal es una tarea compleja y muy técnica que requiere de profesionales especializados y el empleo de todos los medios que el conocimiento y la tecnología

de la administración tributaria estos planes anuales integrados clasifica las acciones a realizar en tres tipos acciones de obtención de información acciones preventivas y acciones de regularización y cobro las actuaciones de obtención de información y las actuaciones preventivas no van a proporcionar ningún importe de fraude aflorado

para la detección del fraude y minorar los riesgos de que se produzca ya que el escenario óptimo para cualquier administración tributaria es evitar la comisión del fraude por su parte las actuaciones de regularización y cobro sí son aquellas actuaciones que permiten regularizar y cobrar las deudas tributarias que han sido previamente defraudadas

situándose en el rango medio de la deuda descubierta en el último quinquenio y representa un cinco coma ocho por ciento del importe total recaudado por las haciendas forales en dos mil diecinueve por tributos concertados de gestión propia durante el año dos mil diecinueve es preciso señalar

diez sentencias condenatorias de los tribunales de justicia por confirmarse la existencia de delitos contra la hacienda pública fijándose una cuantía en concepto de responsabilidad civil de casi veintidós millónes de euros a su vez se ha procedido a la ejecución de once sentencias condenatorias mediante práctica de liquidaciones

de veintiséis coma tres millónes de euros asimismo durante el año dos mil diecinueve las haciendas forales han remitido al ministerio fiscal

contra la hacienda pública por un importe total de cinco coma nueve millónes de euros por tanto el trabajo se está realizando puede mejorarse claro que sí siempre se puede mejorar en la lucha contra el fraude fiscal porque todavía estamos en unos parámetros que deben ser corregidos compartimos que es necesario

para evaluar anualmente la eficacia de las acciones del plan anual conjunto que desarrollan las haciendas forales compartimos que se pueden establecer nuevos modelos de análisis que permitan conocer por cada figura tributaria qué elementos del impuesto son los que se defraudan qué métodos se utilizan

y también podría ser interesante que en el seno de esta comisión se desarrolle y proponga medidas para la cuantificación del fraude si bien también es justo

el incremento del volumen de datos obtenidos por las haciendas forales a partir de mayores fuentes de información especialmente las de origen internacional gracias a los compromisos adquiridos en el seno de la comisión europea y de la

mejores interconexiones y ampliación de convenios de intercambio de información reforzamiento de la colaboración interinstitucional

y desarrollo de proyectos dirigidos al control de las transacciones en efectivo pero si algo es imprescindible en la lucha contra el fraude fiscal es la concienciación de la ciudadanía

en la educación tributaria y en las medidas preventivas y si esto es importante no es menos importante la colaboración por parte de todos

especialmente nosotros debemos contribuir a la lucha del fraude fiscal transmitiendo una idea clara y nítida de unión y de consenso en torno al trabajo

y a la importancia que las administraciones tributarias vascas dan a la lucha contra el fraude fiscal lo ideal es que el fraude descubierto irregularizable fuese cero

eso significaría que tenemos una sociedad plenamente concienciada respecto a las obligaciones tributarias pero sabemos que es una tarea complicada y muy compleja donde los resultados se ven a medio y largo plazo y donde es necesaria la dotación

altamente cualificado y experimentado en esta cuestión por lo que aprovecho también para reconocer el trabajo de los inspectores subinspectores y agentes fiscales que en suma ascienden a ciento treinta y cuatro personas así como la labor de las haciendas forales que vienen realizando distintas propuestas de modificación de las normas tributarias

que la lucha contra el fraude fiscal tiene sin duda una clara prioridad en sus políticas por todo ello el grupo socialistas vascos no va a apoyar la enmienda transaccional ya que atendiendo literalmente a la misma insta al gobierno vasco y a las diputaciones forales en aspectos

y desarrollados en la comisión de lucha contra el fraude fiscal destaco algunos de ellos en cuanto a la participación de más agentes en la comisión ya se planteó

y quedó claro que no era viable puesto que las cuestiones que se trabajan son de un perfil estrictamente técnico y muy especializado dada la complejidad de las mismas

en dos mil dieciocho ya se aprobó en juntas generales la ampliación de las funciones de la comisión para que incorpore entre otras funciones la realización de estudios periódicos

así como su especificación por sectores de actividad económica y sobre la relación con la fiscalía

los datos de los procedimientos puestos en conocimiento de la fiscalía así como los resultados de estas actuaciones de igual forma se recogen tanto los objetivos

se detalla el número de inspectores requerimientos comprobaciones por tipo de impuesto de impreso de sujeto pasivo así como el importe recaudado por tipo de infracción ya sean cuota base imponible o las propias deducciones

y para terminar en nuestra opinión los aspectos propuestos en la iniciativa inicial de elkarrekin podemos izquierda unida y la enmienda que han llegado ustedes

son aspectos más propios de plantear en el seno de las comparecencias donde los representantes institucionales de la comisión contra el fraude fiscal explican

de los planes aprobados y de los resultados obtenidos en las evaluaciones anuales y que recuerdo está pendiente de solicitar para conocer el correspondiente al ejercicio

debió ser debatida el año pasado más concretamente el tres de diciembre de dos mil veinte pero el grupo proponente su debate pensé inocentemente que se debía a la presentación casi en paralelo de otra iniciativa que engloba también el fraude laboral también pensé que posponían el debate

presentada y debatida hoy es idéntica a la que ustedes presentaron en dos mil dieciocho y que como no había sido actualizada con las novedades internacionales

ni por uno ni por otro con lo que nos encontramos hoy con un debate en los mismos términos que el planteado hace tres años con una normativa y con un contexto internacional en materia fiscal totalmente diferente y con esta contextualización de la iniciativa volvemos a escuchar que este grupo eaj y que el gobierno

para erradicar el fraude fiscal miren nuestro compromiso con la lucha contra el fraude fiscal es indiscutible y además no es nada nuevo

y de nuestras propuestas de resolución debatidas en este parlamento en el pleno monográfico sobre fiscalidad de ese mismo año del dos mil trece y este acuerdo y estas resoluciones aprobadas por unanimidad bueno algún grupo no las votó ha sido el germen de todo esto

de la ejecución de planes anuales del análisis de dichos informes y de dichos planes y el compromiso de colaboración

el compromiso del partido nacionalista vasco en la lucha contra el fraude fiscal es

lo que sí podían hacer como sugerencia y para evitar estos debates en este caso queda un poco obsoleto

es solicitar la comparecencia de la comisión de la lucha contra el fraude fiscal informarse de su trabajo y en base a esos datos plantear si así lo estimasen alguna iniciativa pero la última vez que la comisión acudió a este parlamento y fue a instancia creo de la señora pinedo de eh bildu fue en dos mil diecinueve

que sería razonable escuchar activamente a los y las expertas y tomar así nota de los cambios o avances o necesidades que detecten los técnicos los expertos en la materia nosotros creemos que esa es la vía porque hoy solicitan

más coordinación más agentes implicados incluso hoy

que como saben es un debate ya antiguo y que hoy ni siquiera está en el texto planteado más más

también se planteaba más más y siempre más piden lo mismo que en dos mil dieciocho pero sin darse cuenta además

y en el ámbito que ustedes solicitan ha cambiado radicalmente y es por eso que me quiero detener a comentar vuestras propuestas y enmiendas y aunque no he visto o que no han defendido en algún detalle sus puntos de la enmienda o de la transaccional sí que quería comentar algunos puntos

para que vean por qué no apoyaremos su propuesta aunque estemos obviamente

su posición de que evidentemente hay que luchar contra el fraude fiscal primero que la comisión de lucha contra el fraude fiscal es una comisión técnica no es una comisión política

que un plan de lucha contra el fraude fiscal como el que tenemos

como es la tributaria y por ello yo les pregunto si no consideran que la mejor opción es esta

quienes proponen los planes de actuación y en la que además están colaborando los jefes de inspección de las diputaciones forales yo

por lo menos no veo mejor sitio una comisión técnica y coordinada y que escucha a todos los agentes también a los que ustedes proponen a los profesionales en la materia a los sindicatos asociaciones entonces el canal

está abierto solicitan creo que eh bildu y elkarrekin podemos más informes yo simplemente ya han salido también creo que lo ha comentado la señora pérez

sobre la medición del fraude fiscal elaborado por profesores de la upv es al que ustedes aluden y que concluyó que la cav está mejor que otras en comparación el de dos mil siete el informe de economía sumergida de bizkaia o

para la medición de la economía sumergida punto que se sugería en ese informe que también ustedes han aludido

informazio truke hori egotea el convenio marco de intercambio de información entre las diputaciones forales y el gobierno vasco con la agencia tributaria para los intercambios de información en cuestiones de inspección estas se coordinan con la agencia tributaria ya saben en las reuniones que se llaman las actas únicas y también con otras reuniones entre las jefaturas de inspección

también con la inspección de trabajo estatal y la inspección de trabajo del gobierno vasco un asunto este último sobre el que ya

que ni eh bildu ni podemos apoyaron en el que en nuestra enmienda ratificábamos la importancia de la colaboración de las campañas planificadas con la inspección y de seguimiento de los expedientes de fraude

en una iniciativa previa y en este sentido señor gordillo sí que

no me ha convencido hoy en el debate con lo que no voy a cambiar mi posición

si sería mucho más fácil si las instituciones forales les dejasen participar en los foros fiscales internacionales

no participan y en el ecofin a regañadientes y usted sabe que las instituciones forales las vascas tienen mucho que aportar y con mucho valor por tanto

que eso seguro que ayudará a mejorar nuestros planes y la de las otras instituciones eta jarraitzeko

debe acompasarse con formación y concienciación y ahí están también lo ha comentado algún portavoz el proyecto de educación tributaria el proyecto ticketbai que permite a las haciendas forales controlar los ingresos

y en esa misma línea de control la implantación del sii el suministro de inmediata información

de manera más efectiva y para ejecutar todo este programa

yo solo daré un dato y es comprobable las haciendas forales están incrementando los efectivos puestos al servicio de la inspección tributaria en general y de la lucha contra el fraude fiscal en particular lo que también aporta un mensaje claro social claro y nítido un mensaje social claro y nítido en relación con la importancia de las administraciones tributarias vascas

buruzko eguneraketa eskatzen dozuenean la norma foral general tributaria ya está actualizada a los casos de delitos fiscales los casos de simulación o sea la norma es más dura con la última reforma de la norma foral general tributaria pero si bien es cierto y ya amaitzeko

no obsta para que compartamos su inquietud respecto al fraude fiscal al fraude no se le puede dar tregua hay que trabajar desde todas las instituciones para su erradicación y ahí sí estamos completamente de acuerdo colaboración y coordinación no estamos de acuerdo en el método o

a un plan elaborado por personal técnico a un criterio fijado por una comisión técnica pero sí compartimos que hay que trabajar

en coordinación y en colaboración para la erradicación del fraude fiscal

gracias señora presidenta vamos a ver por empezar con el señor gordillo decirle que

apreciaciones en primer lugar una relacionada con la manera en la que usted plantea que podemos evitar digamos la evasión fiscal que es pues básicamente como hablamos o he hablado en mi intervención sobre las grandes empresas y los grandes patrimonios bueno pues igual la fórmula para que no

tanta carga impositiva y que tal vez si no se les piden tantos impuestos

seguro que sí que se quedarán aquí y si les ciframos la carga impositiva en vamos un cero coma poco pues sí seguramente tributarán aquí y si somos un paraíso fiscal pues efectivamente tributarán aquí

no creo que sea la forma y luego se ha referenciado en la seguridad jurídica y además

la derivación de inversiones en renovables a otros países básicamente por la normativa que el gobierno de españa

ha tramitado recientemente hombre

el gobierno de españa o cualquier gobierno con

a determinadas cuestiones de determinadas empresas o determinados particulares por el interés general si esa afectación se produce entonces estamos

en fin distorsionando la seguridad jurídica yo la verdad es que no

en cualquier caso sí que estoy de acuerdo con usted y que creo que es un poco el denominador común de prácticamente todas las intervenciones

de la realidad de la comunidad autónoma del país vasco así como incluso de la realidad estatal que requiere de instrumentos que figuran en la transaccional y también figuran

de las portavoces de los grupos que sostienen al gobierno y es que se requiere de estrechar la coordinación

determinadas administraciones e instituciones así como el intercambio de información en cualquier caso

no he entendido demasiado tal vez me lo puedan explicar ahora parte de la intervención de las portavoces que sostienen al gobierno en cuanto a que parece que hay pasos que dar en combatir el fraude fiscal pero a su vez prácticamente casi todo lo que figura en esta transaccional que es básicamente una

en cuanto a mayores recursos mayor relación y colaboración entre instituciones y administraciones e incluso mayores planes específicos

pues díganme ustedes entonces qué es lo que hace falta es decir si no hace falta estrechar la colaboración entre

si no son necesarios más planes específicos contra el fraude

a un acuerdo pero la realidad es que básicamente han dicho que es extemporánea pero a la vez han venido a decir que luchar contra el fraude es de plena actualidad pero la iniciativa es extemporánea

y luego por otro lado viene a decir que es necesario impulsar determinadas iniciativas que figuran en la transaccional pero a su vez consideran que todo lo que figura en la transaccional está hecho entonces no llego a entender un poco

del discurso en cualquier caso nosotros y nosotras como ya he dicho en mi primera intervención no será en esta ocasión pero

posibles iniciativas que mejoren la lucha contra el fraude y si la iniciativa tiene que ser como ustedes plantean a través de la comparecencia de expertos en esta cámara
pues oiga del mismo modo que podemos solicitarla nosotros y nosotras háganlo ustedes eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

simplemente intervengo para reafirmar los argumentos lo cierto es que

en lo que pensaba inicialmente es una pena que no le haya convencido porque

y sobre todo el argumento es contradictorio porque si dicen los grupos que sostienen al gobierno que ya se está haciendo aquí todos los días votan enmiendas a la totalidad de propuestas que hace la oposición en la que dicen que ya se está haciendo y votan a favor o sea que si es verdad que se está haciendo

que ha presentado en este caso la oposición yo creo y con esto cierro que el tema del fraude fiscal es un tema es muy serio y que tenemos mucho margen de mejora muchísimo de eso depende el tener un lugar atractivo para invertir porque el tema de la seguridad jurídica sobre el que otro día tendremos oportunidad de extendernos es muy importante pero sobre todo el tema de tener

tributario que sea atractivo que sea justo y que sea razonable es fundamental para el crecimiento económico y para el bienestar de todos nosotros seguiremos trabajando en este sentido muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

ya se le ha le ha contestado el señor soto a mí también me ha chirriado bastante el tema de aludir a la posible huida de capitales como razón para no

entiendo que es algo que desde el mundo liberal se pone encima de la mesa todos los días pero no creo que sea la manera de construir un sistema fiscal justo y sobre todo

a los fines que tiene que servir pero bueno lo vamos a dejar ahí ni benetan pérez eta berrojalbiz andreen

a varias cuestiones sobre la comisión le tengo que sí señora berrojalbiz

porque creo que la mayoría de las veces cuando han venido ha sido porque euskal herria bildu ha pedido que vinieran a explicarlo a explicar su propuesta y generalmente he sido yo

la realidad es esa pero eso también creo que es significativo creo que también es una cuestión que tenemos que

encima de la mesa intercambio de información me hablaban

ni siquiera hablaban el mismo idioma otra de las grandes lacras que tenemos en este país que entre las diputaciones forales no hablan el mismo idioma y claro pues a eso también hay que hacerle frente estoy de acuerdo con usted

en varias ocasiones encima de la mesa y el consejero sabe que hemos estado hablando de esos temas

es que pedimos cosas en esta propuesta sin escuchar a la comisión porque si algo ha hecho esta parlamentaria es escuchar a esa comisión desde el mismísimo primer momento que se formó esa comisión que estábamos aquí y escuchábamos lo que decían y hemos escuchado

de reuniones de este parlamento y hemos escuchado como nos decían que efectivamente tenían necesidades de personal que efectivamente hacía falta personal especializado y que

pero nos vamos a quedar tranquilos con eso nos vamos a quedar tranquilos

ya decía que estábamos mejor que en el estado eso es para estar tranquilos yo creo que no yo creo que no pasa nada por poner

que hay que avanzar en la lucha contra el fraude fiscal porque es un compromiso de toda la sociedad y creo que todas las instituciones tenemos que dar ejemplo con ello y creo que hoy

no ponen una propuesta encima de la mesa ante una propuesta en relación al fraude fiscal flaco favor está haciendo a esa lectura por parte de la sociedad de una unidad en la acción y en la lucha contra el fraude fiscal

seguiremos trayendo propuestas como ha dicho el señor soto nosotros

que estará ahí encima de la mesa en algún momento porque seguimos pensando que es fundamental que es fundamental que se haga un análisis independiente también del fraude fiscal creemos que es fundamental y que hay que avanzar en ello y no podemos dar por hecho todas las cosas no se puede decir todo esto se está haciendo porque aunque se estén haciendo algunas cosas que es cierto

se están dando pasos pero se pueden mejorar las cosas porque la realidad es que el fraude fiscal sigue campando a sus anchas y sigue existiendo y si no queremos verlo

aflorado cada año pero es que no se trata de eso se trata como decía la señora pérez de poder conseguir que en un momento podamos decir eh ni un euro pero no porque no hayamos mirado

que eso ya sé que es una utopía probablemente pero debemos de ir en ese camino porque lo importante no es solo el fraude fiscal que aflora sino el fraude fiscal que se evita que se haga eso es lo importante el que se evita que se cometa el fraude que se evita que se cometa porque ese es el que

sociedad va a tener mucho mayor impacto yo creo que hoy se pierde una oportunidad de dar un mensaje a la sociedad de unidad de acción en contra de una de las cuestiones básicas porque el fraude fiscal no es solo que unos no paguen es que todos los demás perdemos un montón de dinero para hacer todas esas políticas públicas tan necesarias en este país y creo que este año todavía han sido mucho más evidentes esas políticas públicas y la sociedad tiene conciencia de ello por lo tanto debemos de responder a la sociedad en el mismo nivel

manifestando el compromiso del partido nacionalista vasco para luchar

y ese compromiso no queda de lado porque no hayamos presentado enmienda

nuestra voluntad y la del gobierno es la de seguir impulsando la colaboración y coordinación

y mejorando y profundizando en los sistemas de intercambio de información

pero usted cree que viendo lo que dice nuestro programa que presentar una enmienda diciendo esto

que lo que enmendamos en la iniciativa sobre el fraude fiscal y laboral y que ustedes elkarrekin podemos y eh bildu votaron en contra ustedes que nos apoyarían

tenemos estos precedentes nosotros ejecutamos nuestras propuestas

yo lo que he dicho es lo que se hace y hacia dónde tenemos que ir

sobre este asunto lo que he dicho que no es a vuestra propuesta concreta

sino a vuestra propuesta que no estamos de acuerdo en vuestra metodología no significa

que compartamos y que también compartamos de que tengamos que erradicar el fraude fiscal entonces no diga aquí usted que teníamos que mandar un mensaje de unanimidad sobre fraude fiscal que eso lo tenemos todos claro planteen

en el panorama actual internacional ahí empezamos a hablar

que usted dice sí nosotros hemos hablado mucho con ellos ya desde el dos mil diecinueve

de la unión europea beps no me diga usted que está actualizado cuando incluso el texto de la iniciativa es igual que el texto del dos mil dieciocho

no y respecto al trabajo que este órgano desempeña y

me refiero al tercer punto de su enmienda primero que lo que se analiza por la comisión

son los informes y no los planes y como ejemplo de información analizada

información de cuentas financieras de las instituciones financieras del resto de estados miembros toda la información de tax sideapa transfronterizos que viene de la dac seis y de la acción cinco del plan beps

intercambia información sobre en el ámbito de por tanto

por lo que he dicho anteriormente dos que los indicadores que usted echa de menos yo los he visto y están en el informe anual y que también

pero respecto de la cuantificación que repito sí se cuantifica creo que la reflexión debería ser más cualitativa y creo que lo ha comentado en la primera intervención la señora pérez que no es un yo creo que no debería ser un tema cuantitativo sino que no es una cuestión de importe y que de hecho lo ideal es que

significaría que tenemos una sociedad plenamente concienciada pero por desgracia pues eso no ocurre y sin embargo pues debemos seguir luchando para que eso pase y en ello estamos empeñados en el partido nacionalista vasco

señora presidenta si los grupos proponentes no tienen

de los puntos uno dos seis por un lado y tres cuatro cinco y siete por otro

nos insistieron nos subrayaron la importancia de informar informar a la ciudadanía sobre el nuevo derecho que la ley de regulación de la eutanasia

una amplia campaña mediática en diferentes medios de comunicación explicando aquellos aspectos que la ciudadanía debe conocer en qué consiste el derecho

para la elección de la profesional o el profesional sanitario etcétera por supuesto que eso implica también que se refuerce el registro de voluntades

para ello y de paso pensamos que este debate el debate de hoy y que el tema

no se han completado hoy totalmente sin ir más lejos en españa todavía hoy tenemos rey pero no solamente la jefatura del estado donde este anacronismo esta falta de madurez histórica se manifiesta también pasa por ejemplo

de la persona para decidir sobre su propia vida y aquí es verdad que existen fuerzas reaccionarias que están empeñadas en tutelar

en españa padecer una enfermedad dolorosa e incurable suponía de facto una condena

cruel y doloroso que privaba a las personas de su dignidad ayudarles

ayudarles a cumplir su voluntad de poner fin a su vida era delito

por fin se revirtió esa injusticia y con el impulso decidido de unidas podemos españa se convirtió en el quinto país del mundo

egindako bilera el gobierno vasco se reunió

y acordó integrar las declaraciones previas y voluntades anticipadas recogidas por la iglesia en el historial clínico de cada paciente

siete barra dos mil dos de voluntades anticipadas ya recoge el testamento vital

y esta misma ley describe la autonomía personal como un valor necesario en las relaciones entre los profesionales sanitarios y los pacientes entonces por qué por qué y no entendemos por qué este gobierno está propiciando que la voluntad de las personas esté intervenida por la iglesia católica

aprobado el señor munilla que es el obispo de donostia

afirmó que esta ley era la expresión de una profunda

generada por y atención la crisis de la figura paterna claro evidentemente nosotras no compartimos

y menos esa visión de un padre que considera el sufrimiento humano como una condición salvífica

jerarquía eclesiástica es la que se ha opuesto en tantas ocasiones a derechos individuales y colectivos que nos permiten avanzar como sociedad y ser más libres

eman dion bitartekari rol hau en todo caso

vayamos ir al grano la aplicación de esta ley

ya que la aprobación de la ley obliga a las comunidades autónomas a tomar las medidas necesarias para el ejercicio del derecho se trata de medidas de carácter organizativo presupuestario de información y de formación y para ello para que esto pueda llevarse a cabo nosotras creemos que es importante que es necesario que se den una serie de pasos y es lo que nosotras queríamos proponer a través de nuestra enmienda en un principio

que concrete las vías para plantear la solicitud a quién dirigirse

y las formas de comunicación dos pensamos que es importante informar a la ciudadanía sobre este nuevo derecho que hasta ahora no conocía y que se le va a reconocer

sería importante hacer una importante una amplia campaña mediática tres para hacer efectivo este derecho también es necesario que se impliquen las administraciones locales para que puedan asumir las responsabilidades en la difusión de este derecho a través de sus propios dispositivos asistenciales como por ejemplo el personal de trabajo social cuatro también pensamos que es muy importante que es urgente la formación del personal sanitario y el refuerzo de la atención primaria

habilitación de un tiempo y un espacio de consulta que garanticen a las y a los profesionales implicadas condiciones suficientes para una buena atención cinco para evitar que este derecho se convierta en un camino de obstáculos creemos que el gobierno vasco debe también elaborar instrumentos como

guiados o documentos informativos que simplifiquen la documentación que los y las profesionales deben utilizar en las diversas etapas del proceso de la prestación

la posibilidad de objeción de conciencia en su artículo dieciséis punto uno y establece que las administraciones deben crear un registro de profesionales que ejercitan la objeción de conciencia en la prestación de ayuda para morir

lo que no puede es amparar posiciones que sean discriminatorias o defensivas

o en lugar de la asistencia las administraciones tienen que tener previstas las medidas

de la adecuada asistencia y para ello creemos que es necesario que exista un protocolo para que en caso de producirse una situación de objeción se garantice en todo caso

la prestación de este derecho a morir hau guztia hau

ya ha tenido que traer a un debate como este a sus fantasmas al debate el rey

multinacionales pero igual en la réplica las trae aquí al debate mire

los miembros que apoyan al gobierno dirán pero el gobierno se reúne con los obispos y con otros colectivos con los que él decida reunirse bien está bien nos parece bien y si puede colaborar mejor mejor porque hay mucha gente que se fía mucho de los obispos aunque a usted no le parezca hay mucha gente y es mejor que los obispos y la iglesia

consumido además buena parte de su tiempo en esta intervención a hablar de la iglesia y de los obispos

tendría otros argumentos efectivamente la enmienda de transacción que han presentado no aporta nada está bien claro no aporta gran cosa pero

desde luego a los señores del pnv y el psoe nos parece bien que colaboren con los obispos nos parece bien

ayuda a la gente a estar bien informada y a saber lo que tiene lo que puede hacer nosotros no es un debate para entrar en la cuestión de fondo en relación con la eutanasia que ha tenido su recorrido y todavía tiene su recorrido porque

partidos políticos que lo componen tienen también diferentes sensibilidades pero bueno

que está ahí y desde luego en ese sentido de lo formal

en la moción de la señora ubera ahora definitivamente ha sido una enmienda de transacción y en la enmienda de totalidad que presentaba la señora gorrotxategi y no lo hace precisamente por eso por cuestiones más de forma es una

no aporta nada desde nuestro punto de vista una moción además

que la ley orgánica tres barra dos mil veintiuno que establece actuaciones obligaciones a las administraciones competentes eso es una

obligaciones y esas actuaciones y por eso

inicial si ya existía un mandato legal

precisamente los extremos que se recogen en la moción en esos mismos extremos es donde tenía que actuar la ley orgánica

que afectan al servicio nacional de salud en este caso el servicio vasco de salud a las comunidades autónomas y bueno

y además atendiendo a los profesionales con los expertos no sé por eso al principio pues nosotros planteábamos que o pensábamos que bueno que el gobierno vasco

de la moción que se movía en el incumplimiento por lo de la comisión

de los proponentes de se desconfiaba de su posible actuación en relación con este tema

o tutelar la actuación de las autoridades sanitarias porque las cuestiones de las que hablaba las mociones

ya estaban contempladas en la propia ley orgánica y eso es así porque tenía que hacerlo

una pregunta sobre la creación de la comisión de garantía y evaluación en materia de eutanasia en euskadi a través del decreto ciento cuarenta y cinco barra dos mil veintiuno de veinticinco mayo sobre su composición nos interesábamos a ver qué se estaba haciendo

o sea que está claro que todo eso son obligaciones del gobierno vasco en cumplimiento de la ley tres barra dos mil veintiuno o sea a algunos no nos gusta esta ley a otros sí pues bueno pero

la enmienda de transacción que han firmado yo creo que se queda en una declaración general con algunos elementos además desde nuestro punto de vista de poca seguridad jurídica de poca seguridad jurídica en una cuestión que exige importantes garantías

de lo que es el ámbito profesional con asociaciones proeutanasia es que no es seguridad jurídica eso es que estamos hablando de una cuestión de relevancia por las garantías que exige es decir el hecho vamos a colaborar con las asociaciones proeutanasia pues yo creo que no es seguridad jurídica y digo yo

y los profesionales sanitarios y los expertos integrados en el sistema vasco de salud yo creo que ese es el elemento fundamental la colaboración pues bueno

no sé pero no como un elemento esencial en el desarrollo de este proceso y de esta ley

determinadas formas de hacer de la administración para aplicar esto que se ha considerado por ley un derecho o sea que no estamos de acuerdo con eso y además

esta es una cuestión que no obedece o que no

de hacer a través de campañas mediáticas como ustedes lo reclaman la información de estas características la tienen que dar expertos la tiene que dar el sistema sanitario cuando se pida esa información eso es lo fundamental y eso es lo referente ustedes hablaban en las enmiendas

en la enmienda de totalidad y en la moción inicial de obstáculos

por eso decía que se desconfiaba de la actuación obstáculos no lo que son lo que tiene que haber son garantías a ustedes a las garantías de las que habla la ley

porque la ley dice muy claro que han de establecerse garantías para que la decisión

protegida por tanto de presiones de toda índole que pudieran provenir de entornos sociales económicos familiares desfavorables e incluso de decisiones apresuradas

las garantías jurídicas fundamentalmente legales normativas y además personales

o sea que tampoco estábamos de acuerdo desde luego en esa cuestión para finalizar mi grupo a la vista

y hemos presentado una enmienda de totalidad porque sí que entendemos

que la administración sanitaria en este caso pus nos diga lo que está haciendo

de la creación de la comisión de evaluación ya contestó cómo estaba formada y composición pero bueno puede remitir y es lo que pedíamos nosotros un informe

por la comunidad autónoma vasca en el desarrollo de la ley orgánica tres barra dos mil veintiuno es más que nada saber cómo va ese proceso vuelvo a decir

todavía tiene algunos alguna andadura jurídica en tribunales veremos cómo termina pero en cualquier caso entiendo

la moción que ustedes han presentado muchas gracias eskerrik asko barrio jauna mistoa

gracias señora presidenta confieso que me resulta complicado debatir sobre cuestiones como las que hoy se plantean por llevar implícita además una contradicción la de un partido de ley como es vox al que no le gusta en absoluto la ley en vigor en este caso la ley de la eutanasia y me explico

lo cual no nos impide defender opciones diferentes a las que defienden determinados textos legales es decir

la de otros partidos una de las primeras medidas que vamos a promover

la derogación de una ley que consideramos peligrosa y fruto de un pacto empeñado en hacer de este tipo de cuestiones una seña de identidad de la izquierda en cualquier caso en vox no estamos dispuestos a allanar el camino hacia el suicidio asistido porque somos firmes defensores de la opción vital

nadie es dueño de la vida ni siquiera la propia persona en eso reside la dignidad de la persona fundamento del orden social como recoge nuestra constitución en el artículo número diez interesadamente olvidado por los promotores de esta ley

ni uno mismo es un valor objetivo que reconoce nuestro propio ordenamiento y considerarlo de otra forma

en este sentido creo que unir la dignidad a la calidad de vida es extremadamente peligroso quien defiende esta asociación parece defender que cuando el bienestar decae la vida pierde su dignidad

digna sin detenerse en el riesgo de considerar a determinados enfermos como personas con vidas indignas

de todos los recursos existentes sanitarios y sociales para mitigar su dolor y sufrimiento a juicio de vox el ser humano jamás ha de ser considerado como una carga

el bien común nos exige a todos hacer todo el esfuerzo posible para aliviar el sufrimiento de las personas enfermas invirtiendo de forma decidida en cuidados paliativos apoyando de forma decidida a la familia al entorno

dicho esto y reconociendo que es mucho el camino avanzado consideramos

para reducir al máximo el sufrimiento de las personas estén o no en la última etapa de su vida ligado a esta cuestión considero fundamental colocar el radar en dichas administraciones

identificarlas y mantenerlas localizadas para realizar un seguimiento

paso previo para destinar a cada una de esas personas todos los recursos que necesite para mitigar su dolor y sufrimiento también el de sus familiares y entornos más próximos hay otra cuestión que se ha de abordar en debates tan sensibles como el que ahora mismo se está produciendo y es el derecho de toda persona a la objeción de conciencia especialmente de aquellos profesionales sanitarios a los que se podría pretender obligar

en contra de sus más íntimas creencias lo mismo que las administraciones y determinados partidos políticos se erigen en garantes de los derechos de quienes desean poner fin a su sufrimiento deberían demostrar una gran sensibilidad hacia toda esa persona a la que esta legislación

éticos morales y religiosos soy consciente de que esta no es la posición mayoritaria en esta cámara pero confío que la mía y la de mi partido sean igualmente respetadas

y aunque sean contrarias a nuestros principios y valores creo que este tipo de ley lo requiere muchas gracias eskerrik asko martínez andrea euskal sozialistak

gracias señora presidenta cuando estudié

a las funciones del derecho dedicamos una clase entera al derecho como factor de cambio social y es bastante fácil de entender

en el que estamos aquí de parlamentarios y parlamentarias que hemos sido elegidos libremente por ciudadanos y por ciudadanas es decir por la sociedad

de cambio social en la medida en que por la materia que legislan

toma de conciencia sobre nuevas y legítimas necesidades que tiene la sociedad y a mí me van a permitir pero como socialista me enorgullece esa

a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas sí pero también está construyendo una sociedad más justa más equitativa más igualitaria en resumen

a mí me parece terrible cuando desde determinados grupos de la derecha y de la extrema derecha se ha pretendido y se pretende contraponer el derecho a la vida y el derecho

y no es así porque la ley de eutanasia se asienta sobre la necesaria compatibilidad entre principios básicos

tales como los derechos fundamentales a la vida la integridad física y moral sí pero también la dignidad personal la autonomía de la voluntad y la intimidad oigan no se puede jugar con el dolor

individual subjetivo de personas que sin estar en un proceso abocado a una muerte inminente sufren una enfermedad grave

sufrimiento insoportable y deciden solicitar y recibir la ayuda para morir anticipadamente los socialistas presentamos en el congreso de los diputados la proposición de ley de regulación de la eutanasia porque creemos que es un derecho de las personas poner fin

y autonomía preservar su integridad y su dignidad y no obligarles a vivir en malas condiciones una proposición de ley que encontró muchos aliados

porque la necesidad de regular la eutanasia es compartida por una abrumadora mayoría social de nuestro país y esa reflexión la compartimos también una grandísima mayoría de este parlamento vasco que al igual que nosotros los socialistas se alegran de contar ya por fin con una ley

muy amplio consenso social y que permite que una vida digna pueda terminar también dignamente una ley para el supuesto en el que una persona sin posibilidad de curación y en circunstancias concretas pueda combinar el derecho a la vida el derecho a la libertad y la autonomía de la persona

pasando por encima de la propia voluntad de cada persona y desde el pasado veinticinco de junio esta ley es una realidad

que en su aplicación y desarrollo este gobierno vasco del que también formamos parte los socialistas es y seguirá siendo un aliado lo digo porque el departamento de salud ya se posicionó por escrito el pasado veintisiete de abril a favor

y la calificó como muy garantista tanto en relación al derecho de la ciudadanía a obtener las ayudas médicas para morir como en relación a los aspectos de seguridad clínica y jurídica de pacientes y profesionales y como no podía ser de otra manera desde ese primer momento

estamos pendientes de que se dé fecha a la consejera para explicar el despliegue de esta ley ante la comisión de salud lo solicitó el pasado veintinueve de septiembre y fíjense igual le hubiera sido prudente esperar a esa comparecencia y así tener actualizada y de primera mano la información

y creemos que puede estar bastante superada ya pero a pesar de no haberse sustanciado la comparecencia

en relación al despliegue de la ley en euskadi la tenemos gracias a las respuestas que hemos recibido a preguntas por escrito y solicitudes de información y también en base a la información a la que cualquier ciudadano puede acceder buscando eutanasia euskadi en cualquier buscador de internet y encontrándose con una página web

estableciendo precisamente la resolución de las dudas que esta ley pueda generar

que se ha procedido a la sensibilización y publicación de información pedagógica en las páginas del departamento de salud

en esas páginas se apunta también la virtualidad de expresar

que había planteado podemos sabemos también que está creado el registro de objetores de conciencia o que en el ámbito formativo con el apoyo de los comités de ética asistencial se presta al personal sanitario y a los colegios profesionales de medicina y de enfermería la información sobre la ley desde los puntos de vista técnico y jurídico y que también se han abordado los cambios en la historia clínica electrónica para garantizar la confidencialidad de los registros o la creación de los nuevos formularios etcétera etcétera es decir sabemos que el gobierno vasco está desarrollando la ley tal y como la propia ley prevé que hagan las comunidades autónomas y también sabemos que lo está haciendo en red y dentro de los parámetros establecidos con el ministerio de sanidad que no es poco

tal y como se ha reconocido por parte incluso de la propia asociación derecho a morir dignamente que el pasado siete de octubre en un medio de comunicación valoraba de manera muy positiva

y que todas las personas que cumplen con los requisitos que la ley prevé han podido cumplir su deseo de ahí nuestra enmienda hablamos de una ley en vigor

que establece en la propia ley lo que tienen que hacer las comunidades autónomas sabemos que el gobierno vasco ha sido proactivo en hacerlo y sabemos que las propias asociaciones

como que en tres meses hayamos sido capaces de garantizar que todas las personas que cumplen con los requisitos contenidos en la ley hayan podido ejercer su derecho

nos parece más oportuno exigir al gobierno vasco que cumpla y garantice en todo momento las obligaciones de su competencia para asegurar el correcto ejercicio del derecho de eutanasia

azaroaren batetik duela hogeita zazpi urte jada y quiero intervenir en este debate con el

mi argumentación en dos partes por un lado mi creencia de lo que estamos haciendo y de que eso que estamos haciendo es bueno para nuestra sociedad

y hacerlo bien mi creencia en que es bueno lo que estamos haciendo decía la sailburu

está en sevilla recogiendo un premio por la gestión de osakidetza en el ámbito hospitalario pues zorionak osakidetza

que decía la sailburu en respuesta a su interpelación señora ubera que nosotros y nosotras nuestro partido creemos en este derecho que recoge esta ley y por ello participamos en la creación de la norma

creemos que es un derecho necesario dirigido a las personas que pasen por esa difícil situación para que no tengan además que pasar por un sufrimiento también jurídico yo comparto esas razones y tengo otra razón más con forma de vivencia personal como

de los que hoy están aquí y muchísimas otras personas que me impactó directamente ese uno de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro del que antes les hablaba

de una forma cruel también la oscura sombra una oscura asombra el fantasma penal porque esta ley orgánica sobre cuyo desarrollo hoy debatimos tiene una estrecha relación con otra ley orgánica la diez barra mil novecientos noventa y cinco además señora

pero con esta ley orgánica tiene una estrecha relación

código que ha sido reformado por la ley de eutanasia les propongo que hagan un ejercicio vayan al código penal

ciento cuarenta y tres hace referencia a aquellos que inducen o colaboran en el suicidio una persona y establece las correspondientes penas de prisión

con la gravedad que esto conlleva penas privativas de libertad de dos a diez años

al último punto del artículo el cinco el que ha sido introducido por la ley de eutanasia podrán ver

quien cause o coopere activamente en la muerte de otra persona cumpliendo lo establecido en la ley orgánica reguladora

los puntos uno dos tres y cuatro han estado vigentes hasta hace tan solo cuatro meses durante veintisiete años y antes aún peor no existía el punto cuatro seguro que pueden imaginar que podemos imaginar el dolor y la doble condena

aquel código penal seguro que podemos imaginar el sufrimiento de quien ha estado

con su vida volvamos al día de hoy volvamos a la realidad con punto cinco este nuevo apartado cinco es por tanto un precepto penal en blanco

cuya aplicación por los juzgados y tribunales ha de complementarse con las prescripciones de la nueva ley orgánica

y desarrollarla adecuadamente creo en la bondad relativa de las leyes esta es una frase que me gusta mucho que se decía en el mundo jurídico del siglo diecinueve y consideraban una verdad constante que las leyes debían de acomodarse

creo que hoy el ordenamiento jurídico tiene un poco más de bondad relativa con esta ley después de la creencia el deber de hacer la ley de eutanasia atendiendo a las competencias que tiene euskadi en materia de salud obliga a nuestra comunidad obliga al gobierno vasco

en este sentido señora ubera en la respuesta a su interpelación en el pleno del dieciséis de abril la sailburu

y yo de esa respuesta destacaría tres elementos el primero el compromiso con la ley del que ya he hablado el segundo

listado de actuaciones de obligaciones que asume el gobierno vasco la sailburu da un listado detalladísimo no hablarían tanto de un listado sino una serie de bloques bloques que tienen un desarrollo y no los voy a recordar

importantísimos incluso los que nos pueden parecer menos importantes como puede ser el bloque de la tramitación administrativa vemos que

un nivel de dificultad alto y no estoy hablando de trabas burocráticas elementos esencialmente necesarios en una herramienta de estas características y una tercera parte

en esa respuesta que sería lo referido al

el estado actual del cumplimiento de las obligaciones refiriéndonos a abril dos meses antes

y nos decía la sailburu todo esto está diseñado y la ruta está establecida con un grupo de trabajo específico que lleva abordando esta tarea desde la aprobación de la ley estamos en marcha para dar cumplimiento a esta ley y a las personas que quieren hacer uso de ese derecho

es decir más de dos meses antes de la entrada en vigor de la ley este gobierno ya tenía todo previsto y organizado evidentemente señora ubera yo no voy a decirle cómo tiene que utilizar las herramientas de control e impulso al gobierno que tiene a su disposición es su responsabilidad

pero en un debate como este me veo en la necesidad de hacer el análisis de sus iniciativas la utilización de esas iniciativas

registra esta interpelación y fundamentalmente lo que pregunta es qué pasos va a dar el departamento de salud

como he hecho referencia antes en relación a esos tres elementos pero por hacer un resumen del resumen lo que le dice este gobierno es que va a dar todos y cada uno de los pasos necesarios para garantizar el derecho pero también le dice

a mí su interpelación me parecía un poco forzada pero pensé bueno quedará

lo que tuve claro es que en este sentido el gobierno daba más allá de la respuesta que usted pedía

y ese elemento de control lo convierte en un elemento de impulso yo creo que es difícil impulsar algo

que no está es difícil impulsar algo que va más rápido

me parecía un poco atrevido este planteamiento de impulso

en la forma en una redacción tremendamente en el detalle yo sinceramente no me veo en disposición de

y de dirección cómo deben hacer tan al detalle su trabajo

sin embargo curiosamente usted no lleva a debate la moción por lo que

oportuno utilizar esa herramienta de impulso mantiene esa iniciativa en letargo

nos van llegando informaciones por ejemplo la pública del departamento de salud que aquí se ha comentado también

vamos viendo que se van cumpliendo cuestiones y la iniciativa sigue en letargo

sailburu el departamento de salud solicita comparecencia para informar al parlamento pienso yo pienso ya no tiene ningún sentido activar la iniciativa antes

la actualización como decía el señor rico de todo lo que nos van a traer y me equivoco otra vez usted activa la iniciativa y

es que no era necesaria que utilizase esta extraña función de impulso porque sabe que este gobierno desde el primer momento después de la aprobación de la ley mostró su disposición y convicción para trabajar en su aplicación hacerlo con garantías y seguridad y dar la mejor respuesta a todas las personas

con dignidad ese es y no otro el propósito de este gobierno acompañar a todas esas personas

dignas este gobierno cumple desde la convicción

el departamento lleva trabajando desde hace muchos meses para dar esa respuesta legal y segura a una situación terrible para muchas personas

señor barrio empiezo por usted

hablando de obsesiones de cada uno verá solamente le ha faltado decirle decirme

y usted sabe perfectamente que eso no es así yo creo

de animar a nadie al suicidio ni muchísimo menos sino de cumplir con un derecho fundamental que muchas veces las leyes son instrumentos son factores de cambio es cierto pero en este caso es que ni siquiera

en este caso esta ley lo que viene es a acompasar el ordenamiento jurídico a la voluntad mayoritaria de la sociedad o sea que

ahora lo importante es el desarrollo correcto de esta ley desarrollo correcto de esta ley efectivamente y al hilo de todo esto claro plantea y entonces es innecesaria esta moción no viene a cuento esta moción

y sí me parece por eso que y se lo diría tanto

quedarse solamente en el cumplimiento de las obligaciones en que el gobierno debe cumplir con las obligaciones que establece la ley es quedarse un poquito corto porque no nos permite poner sobre la mesa determinadas cuestiones que es lo que yo hoy he querido hacer aquí y en este sentido ya

claro es verdad y lo decía el señor barrio el gobierno vasco tiene todo el derecho del mundo a reunirse con los obispos claro que sí

la cuestión es cuando se reúne con los obispos para tomar decisiones que pueden interferir en la ejecución correcta de un derecho fundamental

que intenta materializar un derecho fundamental y en este caso tal vez adquiera más sentido del que podría pensarse

pero tendríamos que ver cuál es de qué manera se ha acogido sus demandas porque yo creo y este es parte solo parte hay muchas más cosas pero esto es parte del debate que yo quería

la cuestión es dónde ponemos el foco cuando hablamos de desarrollar la ley de eutanasia la ponemos en los obispos o la ponemos en derecho a morir dignamente yo creo que la diferencia es sustancial y más allá de confiar en que la labor del gobierno vaya a ser o mala en la ejecución de esta ley yo creo que poner el foco en el lugar debido es una cuestión muy importante que es precisamente de lo que yo quería hablar hoy

con su permiso señora presidenta desde el escaño brevemente

y en la regulación y en cómo se desarrolla una ley yo creo que

como todo eso vuelvo a decir la iniciativa que ustedes presentan es innecesaria ya no me diga usted que yo le iba a decir y no lo he dicho de apología del terrorismo ni mucho menos de apología del suicidio ni mucho menos yo no he hablado

usted ha sido la que aprovechando el tema de la eutanasia ha hablado del rey y de los obispos ha hablado usted es decir en una cuestión que usted lo ha hecho o sea que a mí no me diga nada yo respeto mucho su posición pero en ese sentido me ha resultado chocante

lo he dicho la posición de mi grupo es de todos conocida el partido popular votó en contra de la ley de eutanasia y ciudadanos votó a favor y eso es lo que

un recurso ante los tribunales constitucionales y está ahí y en ese sentido pues lo que hacemos es respetar todo

aprobada y entonces y eso es donde ponemos nosotros el foco no sé lo que pasará en el devenir del proceso jurídico constitucional pero en este momento hay una ley

hemos hecho preguntas y en ese sentido vuelvo a decir la

porque desarrollar la ley es una obligación del servicio vasco de salud y ustedes hablan pues de una especie de colaboración con entidades privadas

o una campaña informativa son otras cosas lo fundamental es digo yo pues cumplir la ley los artículos de la ley y en ese sentido es donde yo me refería y sobre todo a lo que ustedes han llamado obstáculos o esa desconfianza que mantienen en la actuación

hemos querido llamar garantías garantías como dice la ley garantías de que

y ese es el elemento fundamental por eso mismo es decir es innecesaria la iniciativa que ustedes presentan que supongo que será pues para estar ahí para sacar un poco

hay que tener en cuenta a la asociación derecho a morir dignamente pero no a los obispos yo lo que quiero decirle y trasladarle es que hay que tener en cuenta todas las sensibilidades señora gorrotxategi si hablamos con la asociación derecho a morir tendremos que hablar también con la asociación derecho

por otro lado que el gobierno vasco se reúna con los tres obispos creo que es fundamental puesto que representan a una gran parte de la población si tenemos en cuenta que la mayoría de la población tanto vasca como española

muchas gracias eskerrik asko martínez

gracias señora presidenta señora gorrotxategi

pero fíjese yo digo que es factor de cambio social

y la ley es el verdadero factor de cambio social es verdad

que recogemos un amplísimo sentir de la sociedad española y de la sociedad vasca en esta ley por supuesto pero el hecho de que ya contemos con esa ley hace que por fin ese gran espectro social pues tenga el instrumento para poder desarrollar

ese derecho no nos quedamos solo con la ley y con el cumplimiento estricto o de lo mínimo imprescindible

yo creo que hay que reconocer que el gobierno vasco ha sido proactivo en el apoyo de esta ley incluso haciendo públicamente un posicionamiento a favor de la misma cuando no era una realidad

los mecanismos internamente dentro de euskadi antes de que incluso legalmente hubiera que hacerlo para tenerlo todo previsto y además ha tenido

lo repito en sintonía con los parámetros establecidos por el ministerio de sanidad que no es poco que ojalá otras comunidades autónomas verdad

parámetros con respecto al tema de las diócesis los obispos no lo enfoque de esa manera

en ese caso yo tendría bastante que decir si fuera así se está colaborando con ciudadanos

punto y esta ley que hemos aprobado ustedes nosotros y la gran mayoría de esta cámara recoge algo muy claro y es que esto es un derecho no una obligación y que hay gente que ideológicamente decidirá no ejercerlo bueno pues de la misma manera

que proteger de igual manera a la ciudadanía que no lo quiere ejercer y hay que verlo con cierta naturalidad y bueno pues esto pasa en países

con plenos efectos bueno pues igual hay que enfocarlo en esa tradición no con que se esté colaborando

que no con respecto a algo que han mantenido tanto la señora ubera como la señora

pues fantástico una campaña de información si ese es el único problema el hacer una campaña de información pues fantástico

les he dicho existe una página web en la que pueden acceder pero además no es rebuscada es que si pones eutanasia euskadi en cualquier buscador

departamento de salud en el que se resuelven todas las dudas en el que incluso se

está muy bien enfocado y además sabemos cuál es el público objetivo

y esa información llega en el momento también que tiene que llegar además de que yo creo que todos nos hemos enterado que en españa existe una ley de eutanasia porque eso lo hemos visto

en todas partes y yo creo que ese no es el problema el problema y vuelvo con algo que le decía al principio y voy ya con el pp y con vox es lo que pueda suceder en otras comunidades autónomas donde gobiernan precisamente fuerzas que han votado en contra de esa ley que incluso la han recurrido ante el tribunal constitucional pidiendo en el caso de vox

de que no se pudiera poner en práctica el matiz lo ha expresado el señor barrio en la última intervención que yo le iba a apuntar en la primera

que eso ya además de sensibilidad produce algún

somos todos más dignos con esta ley conseguimos lo he dicho al principio

dignamente y yo creo y lo voy a repetir que esto es un motivo de orgullo yo como socialista como miembro del partido socialista estoy profundamente orgulloso de esto

como miembros del gobierno vasco no les quepa ninguna duda que nosotros también hacemos junto con el partido nacionalista vasco que este gobierno sea un aliado para el cumplimiento de esta ley porque nos lo creemos porque lo defendemos simple y llanamente gracias

tres cuestiones que quería destacar y precisar una cuestión casi de método o de procedimiento la señora gorrotxategi también hacía mención

necesaria o innecesaria que no viene a cuento esta iniciativa etcétera a ver hay una cuestión la misma señora ubera nos decía se han tomado medidas se han tomado medidas no se han tomado todas las medidas que se podrían haber tomado reconocía que se habían tomado medidas a ver para realizar una función de impulso que era lo que yo

para realizar una función de impulso se necesita saber cuál es la situación de lo que queremos impulsar entonces

trasladando es que en este momento

nos venga un gran volumen de información sobre la cuestión nos parece que no es el momento

para utilizar esta herramienta para utilizar una herramienta de impulso y luego se nos criticaba un poco que nos quedábamos en el cumplimiento o en el planteamiento estricto de la ley como recoge en el artículo o lo que establece la ley como obligaciones que se deben cumplir para ejercitarla en este caso las comunidades autónomas recogido en el objeto de la ley en el artículo uno no

habría que esperar como no conocemos esa realidad en detalle necesitamos toda esa información volvemos a esa situación decimos

eso que se haga lo que tenemos claro que se tiene que hacer

que ya se ha hecho que sería el punto segundo de mi reflexión porque en la víspera de la entrada en vigor de la ley el propio departamento comunica

para poder ofrecer esta prestación a toda persona que lo solicite que lo solicite ofrecer a quien lo solicite remarco porque no estamos ante una obligación

morir y vivir con dignidad que usted también ha dicho y en tercer lugar algo también a mi juicio importante

y me parece interesantísimo una reflexión que en una revista de la propia asociación a la que usted ha hecho referencia

nos decía y es una entrevista a una persona que

miembro de la comisión federal de control y evaluación en bélgica veinte años de experiencia en esta cuestión con una ley en vigor del año dos mil

y también presidenta de la asociación por una

y ella decía el titular de la entrevista empieza el trabajo de fondo que es en el que nos tenemos que aplicar

que me parece interesantísimo una evolución hablando de su caso una evolución que se hizo en cierta medida naturalmente basada en qué en que las situaciones nuevas que hemos conocido una vez implementada la ley surgieron siempre de la base es decir de la demanda de los pacientes

en este sentido este gobierno estoy seguro que seguirán trabajando para que esta ley responda a las demandas de la sociedad estaremos

ofreciendo unos cuidados paliativos de calidad y estaremos estarán para ayudar a quien no quiera seguir sufriendo cumpliendo con todas las garantías y con el procedimiento que estipula la ley defenderemos defenderán